titularrak etengabe irailetik izan ditugun titularrak el gobierno vasco da ejemplo con la subida de salarios a los funcionarios

la señora ubera encontrarán ustedes si se han tomado la molestia de leerlas una diferencia

tanto entre la proposición no de ley presentada por el grupo proponente eh bildu

también con respecto a la enmienda a la transacción que finalmente presentamos una diferencia sustancial que se resume fundamentalmente en que no hemos incluido ninguna crítica explícita a la acción y actitud del gobierno respecto a la

en el ámbito del empleo público y respecto a las políticas respecto al empleo público de los últimos años por parte del gobierno y por parte también de anteriores gobiernos no es que desde septiembre aquí hayamos cambiado de opinión

sobre lo que se ha hecho y sobre la actitud que ha tenido el gobierno en esta materia sino que efectivamente nos parecía interesante plantear una transacción con una serie de propuestas concretas

asumibles por el gobierno por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi y por lo tanto pues yo voy a ser claro el objetivo

o al menos con el que viene hoy mi grupo a esta cámara es aclarar si efectivamente el gobierno tuviera

de adquirir compromisos reales aunque insuficientes y desde luego yo sé que para los sindicatos insuficientes y también para mi grupo pero compromisos reales y que pudieran ser asumibles o si por el contrario es cierta son ciertas vamos a corroborar si son ciertas las acusaciones

y de una mala actitud respecto a la negociación en la función pública de la comunidad autónoma desgraciadamente vamos a comprobar porque los partidos que sustentan al gobierno y el gobierno

les enfada esto y suelen recriminarme que confunda los partidos que apoyan al gobierno con el gobierno yo no es que los confunda es que son lo mismo

pues me lo demuestran y bueno a mí me parece coherente yo no voy a reprochar eso lo que sí no voy a aceptar es que a mí me reprochen que los mezcle porque han demostrado que los partidos que apoyan al gobierno no se separan un milímetros de las posiciones del gobierno

se presenta también en este parlamento con la oposición de izquierdas bien

se puede resumir en tres o cuatro elementos una inflexibilidad en la mesa de negociación al presentarse con medidas cerradas

margen de maniobra a los sindicatos para negociar propuestas además cicateras porque si hablásemos de propuestas de máximos que no tienen ya mayor recorrido quizás estaríamos hablando de otra cosa pero tal y como se ha denunciado constantemente son propuestas cicateras

presentando esas medidas cerradas a los medios de comunicación

como si estuvieran siempre situados en el monte pidiendo cosas a todos los sindicatos a los que hacen unas valoraciones más duras a los que hacen unas valoraciones más suaves a los que llevan menos propuestas a las mesas de negociación y a los que llevan más propuestas a las mesas de negociación a todos

que en estos últimos años una actitud cobarde e

desde el año dos mil diez por lo tanto también me referiría a gobiernos anteriores entre otras cosas porque se han excusado en los últimos años constantemente en las medidas tomadas por el gobierno de madrid por el gobierno del partido popular y quizás llevan razón en algunas de ellas

me voy a extender en las medidas que ha tomado el gobierno del partido popular en los últimos años para la limitación

de los empleos públicos pero es verdad también que este gobierno

las posibilidades que había sino que al contrario ha aprovechado esas políticas para hacerlas suyas para hacerlas rápidamente suyas y para aprovechar

las políticas que aprobaba el gobierno del partido popular respecto a esta cuestión eran en gran medida compartidas por este gobierno y por algún gobierno anterior nosotros nos preguntamos

en los últimos años ha habido importantes negociaciones entre el gobierno vasco y el gobierno del estado qué nivel de importancia han tenido en esas negociaciones o cuánto se han puesto encima de la mesa estas cuestiones

afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores también los del sector privado pero en concreto hoy de los del sector público qué peso han tenido

en las negociaciones porque hemos visto como gobiernos del partido popular retiraban recursos de inconstitucionalidad que ayer

con este gobierno dejaban de ser inconstitucionales pero sobre las cuestiones de los derechos de los trabajadores no parece en cambio

nosotros pensamos que lo que ha pasado en los últimos años ha degradado el sistema público en nuestra comunidad hay lo saben ustedes una importante pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores públicos

otros incluso del veinte por ciento nosotros preguntamos sabe el gobierno se ha planteado el gobierno

cuánto es la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores ha querido ir a la mesa simplemente a plantearse

para cuantificar esa pérdida de poder adquisitivo para marcar una hoja de ruta en el tiempo que sea negociada ha habido una pérdida de empleos públicos también en los últimos años y las

no son suficientes para recuperar la pérdida de empleo público que hemos sufrido en los últimos años tenemos unas tasas de temporalidad que no son altas son

entorno al treinta por ciento que nos han supuesto incluso llamadas de atención de la unión europea qué medidas

y por qué cuando llego la crisis y cuando llegaron algunas medidas de madrid teníamos esa alta tasa de temporalidad porque ya la teníamos anteriormente

ha habido un incumplimiento reiterado de los acuerdos que ya había de los acuerdo de dos mil diez en concreto con la cuestión de la externalización

las privatizaciones porque en aquel acuerdo se recogía expresamente

más servicios y se han venido externalizando más servicios de manera reiterada

porque cuando se externalizan servicios de la administración pública de manera reiterada en el tiempo lo que estamos haciendo es privatizar de manera encubierta trabajos que se tienen que hacer desde la administración pública y que en numerosos casos se han demostrado además más eficientes

y que desde luego una cosa tienen indudable cuando se realizan desde la administración pública las condiciones de trabajo de las y los trabajadores son mejores

que se ha seguido retrasando durante los años y que además

al respecto y en definitiva una situación de descontento importantísimo de las y los trabajadores del sector público que este gobierno no ha sido

de afrontar por lo tanto nosotros presentábamos como ya ha explicado también la señora ubera una enmienda asumible con tres puntos concretos para que el gobierno se comprometa a hacer algo que en teoría ha dicho que va a hacer esa subida del uno coma cinco por ciento pero desde el uno de enero con el compromiso de una hoja de ruta que solo se le marca en esta

una hoja de ruta para acordar con los sindicatos cómo y en qué tiempo

y un tercer elemento acordar también con los sindicatos las ope necesarias para recuperar el empleo y reducir la altísima tasa de temporalidad por lo tanto presentamos una enmienda de transacción

asumible por este gobierno pero parece ser que el gobierno los partidos que lo apoyan que son lo mismo

absolutamente vacía de contenido que solo nos marca dos cuestiones que serían lo mínimo que se le puede pedir a cualquier gobierno

en abstracto y que negocie las subidas salariales que correspondan cuáles son las que corresponden sí

nos parece insuficiente y así lo digo a mi grupo le parece insuficiente para los problemas que afrontamos en el sector público y sobre todo respecto en las condiciones de trabajo en el sector público

me parece que sobra no dice nada por lo tanto

defenderemos hoy nuestra enmienda aunque como digo nos parece también que es insuficiente lo más importante es que este gobierno se ponga de verdad en la mesa a negociar con los sindicatos y no a presentarles propuestas cerradas para salir inmediatamente en el teleberri a anunciar
que está proponiendo el oro y el moro eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak castelo andrea

egun on guztioi debatimos hoy una proposición no de ley que presentó el grupo proponente eh bildu a finales de septiembre de dos mil diecisiete

su presentación hay propuestas planteadas o acuerdos ya ha aprobados por este parlamento que trastocan parte

la justificación de la propuesta los socialistas junto con el resto de los grupos

que se presten unos servicios de calidad sobre esto como muy bien se ha dicho por la señora ubera hemos tenido posibilidad de debatir en esta cámara hace escasamente dos meses cuando tratábamos

como expresión de los derechos de ciudadanía y de la posibilidad de ejercer a través de ellos la solidaridad la igualdad y la cohesión social

de las medidas que se adoptaron en el ámbito de la función pública en los momento más duros de la crisis

que se realizaron no solo por los empleados públicos sino por toda la clase trabajadora

es a partir del dos mil dieciséis en cambio cuando se produce la primera subida de los trabajadores públicos se hizo en el dos mil dieciséis se ha hecho en el dos mil diecisiete y se va a hacer también para el dos mil dieciocho nos trasladaban también los propios sindicatos en las comparecencias que tuvimos oportunidad de tener con ellos a primeros de este año que ya en el dos mil dieciséis se había recuperado la jornada laboral de treinta y cinco horas semanales

y en este mes y lo aprobamos en esta cámara se abonará la última parte de la paga extraordinaria

asimismo y también lo conocemos el próximo año se retornará a las aportaciones de itzarri los sindicatos lo consideran insuficiente

y defender las mejoras para las condiciones de los trabajadores públicos lógicamente dentro del marco de la negociación colectiva que ha de darse con la administración

en esta cámara parlamentaria una negociación en la compartimos que ambas partes

y con el objetivo de lograr un buen acuerdo para todos ellos por ello en nuestra enmienda aunque a alguno le parezca vacía de contenido instábamos al gobierno vasco a que en aras a esa buena fe negocie con los representantes de los trabajadores los correspondientes incrementos salariales que continúen garantizando

la prestación de unos servicios públicos bajo criterios de eficiencia de eficacia de calidad con condiciones dignas y estables que permitan afrontar a la administración los retos del futuro pero es verdad que no todo se reduce a parámetros económicos porque uno de los problemas que acosan a la administración

es la alta tasa de interinidad que soporta la administración general del país vasco agravado además por una plantilla con una media de edad muy alta más de cincuenta años porque si el objetivo que todos décimos perseguir es el de una administración eficaz que preste servicios de calidad lo que hay que conseguir es hacer frente

de las plantillas lograr la consolidación de los puestos de trabajo que evite la descapitalización del conocimiento y la experiencia acumulada por trabajadores

acumulan muchos demasiados años como

en muchas ocasiones y hoy lo diré una vez más la administración no se puede permitir el lujo y en esto también compartíamos hace dos meses en esta cámara de perder el conocimiento y las destrezas adquiridas por estos trabajadores a lo largo de los años

porque ello lógicamente incidiría sin duda alguna en la eficacia y en la eficiencia y en la calidad

hemos de prestar a los ciudadanos yo sé que tanto el gobierno como los sindicatos tienen entre sus prioridades la estabilización y el rejuvenecimiento de la plantilla

con ambas partes esta prioridad sobreentiendo que también por lo que ha dicho el portavoz de podemos y la portavoz de eh bildu comparten con nosotros esta

económicas instábamos al gobierno vasco a que siempre dentro del marco

negocie las correspondientes convocatorias de ofertas públicas de empleo con un objetivo muy claro que es atajar la interinidad existente y garantizar el relevo generacional

década saben ustedes lo conocen y no desconocen o no lo pueden desconocer que sobre la mesa de negociación se encuentra en este momento la oferta

sí que es cierto que nosotros creemos que sería deseable un acuerdo con las centrales sindicales que permitiera definir cada una de las convocatorias y determinar con celeridad el número y el tipo de plazas a ofertar en cada sector de la administración igual de deseable

para establecer un procedimiento de consolidación de plantillas y ahí tendremos que utilizar el instrumento que nos pueda ofertar esa ley de empleo público como ustedes han dicho y que nosotros compartimos hay mucha tarea por delante pero con unos protagonistas muy claros y que por mucho que nos pese no somos nosotros sino que son los sindicatos

a pesar de que partimos del mismo punto y que compartimos los objetivos es verdad que no ha habido posibilidad de llegar a una transaccional con el grupo

con nuestros dos puntos no es una enmienda de mínimos sino que es una enmienda con un contenido cierto por lo tanto la vamos a mantener y lo que sí vamos a solicitar

esta mañana debatimos un asunto con el que no podemos estar en desacuerdo la recuperación de la capacidad adquisitiva de los y las trabajadoras públicas

en la fórmula planteada en la iniciativa original y ahora en la enmienda transaccional para llevarlo a cabo

un ejecutivo contraria a que los empleados y empleadas públicas recuperen el poder adquisitivo que tenían previo a la crisis un ejecutivo que por antojo no quiere mejorar las condiciones laborales de este colectivo pero saben en el fondo saben ustedes apuesta firme de este gobierno por la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales para la sociedad en general pero en particular también para el personal público

y mejorar las condiciones del personal laboral del personal público es fortalecer esos servicios públicos tampoco se puede cuestionar el compromiso de este gobierno con la negociación colectiva

un acuerdo siempre es mejor para todas las partes principalmente para los

pero el que no se pueda alcanzar el acuerdo por falta de voluntad o por inflexibilidad en las posturas no quiere decir que no haya habido negociación negociación hay y la seguirá habiendo tampoco podemos olvidar que venimos de una crisis que ha habido muchas dificultades y que ha dejado somos conscientes muchos damnificados en la sociedad en general y

todos hemos y han perdido poder adquisitivo y ahora estamos en la senda de la recuperación pero no se puede pretender tal

que esta situación revierta de la noche a la mañana esto tiene que ser un proceso

límites legales y presupuestarios entre los que destaca la legislación básica del estado que no es una excusa sino una obligación legal que vincula a todas las administraciones públicas y evidentemente no sé si ustedes donde han gobernado señora ubera han sido sus diputados han sido groupies de la loapa

que estos consejeros yo creo que ninguno es es una obligación legal que no es una excusa a pesar de este contexto económico y de los límites legales y presupuestarios el gobierno ya ha adoptado medidas que mejoran las condiciones laborales del personal público

se han dado pasos y se seguirán recuperando los derechos que han sido mermados y muestra de ello

está en los presupuestos que el gobierno vasco acaba de presentar unos presupuestos que están en fase de negociación y que todos ustedes tienen la oportunidad de aprobarlos y que haciendo un importante esfuerzo financiero mejoran sustancialmente las condiciones laborales de

se concretan o hay que destacarlas en tres líneas

de manera provisional y transitoria sin perjuicio de las disposiciones

con lo cual ustedes tienen la oportunidad a través del apoyo a estos presupuestos de que esa subida del uno coma cinco sea una realidad

a partir de enero y no a través de la iniciativa porque realmente la fórmula es aprobar una iniciativa una proposición no de ley la fórmula es aprobar la ley que ya los prevé

de su plantilla se retoman las aportaciones a itzarri prohibidas desde el dos mil doce por el estado se inicia con un cero coma cinco que tendrá vigencia desde enero de dos mil dieciocho con la posibilidad de que el gobierno acuerde una subida hasta el uno por ciento dependiendo o sometido a la negociación colectiva además se van a convocar cuantiosas ope en esta legislatura se parte de un número de trece mil quinientos plazas pero es un número mínimo no es un número cerrado y

se somete a las mesas de negociación correspondientes a la negociación colectiva por lo tanto con las ope las ope son van a ser una herramienta muy potente

de empleo el relevo generacional consolidar el conocimiento y el buen hacer de los que llevan años dentro y reducir la temporalidad y dar estabilidad en el empleo para ello va a ser fundamental la ley de empleo público vasco que como usted ha dicho señora ubera y compartimos

de esta administración por lo tanto constituye una oportunidad está en manos de todos hacer las aportaciones oportunas para que esa ley pueda ser aprobada

con la finalización de la legislatura además de estos tres pilares básicos ya se han recuperado ya ha habido mejoras por ejemplo en la jornada laboral aunque ahora esté

complementación retributiva de las it recuperación de la paga extra de navidad de dos mil doce suprimida por mandato del estado cuestión zanjada este mismo mes en este mismo parlamento y además se han planteado nuevos permisos además por otro lado la iniciativa plantea

que diseñe un plan plurianual para la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años concretando un calendario y unas partidas presupuestarias

lo saben ustedes y también lo saben los sindicatos la legislación básica del estado condiciona completamente a todas las administraciones públicas

que ustedes plantean nos llevaría irremediablemente a la vía de los recursos y las impugnaciones y no se pueden crear falsas expectativas en una cuestión tan seria como las condiciones laborales

a pesar de esto a pesar de este marco que tenemos denunciamos una vez más la política intervencionista del estado en concreto en el ámbito de la función pública cada vez son más materias las que el estado

como legislación básica por ejemplo la jornada laboral el incremento salarial las tasas de reposición

margen de negociación prácticamente la regulación se agota con esa regulación básica pero además

limita la capacidad de autoorganización como todos sabemos limita la capacidad de autoorganización de las administraciones públicas y

en cualquier caso volver a destacar la voluntad y el compromiso del gobierno vasco de exprimir al máximo y de aprovechar todas las oportunidades que esa normativa básica puede aportar para mejorar las condiciones laborales de su plantilla y en esta línea aunque les

con la representación sindical en las mesas correspondientes para reducir los retos que principalmente tiene la administración que son las altas tasas de interinidad

y además solicitamos que el incremento salarial sea negociado en las mesas correspondientes siempre como no puede ser de otra forma dentro del marco legal y presupuestario vigente

la propuesta realista y la propuesta potente por lo tanto ofertas públicas de empleo

no se puede apoyar esta enmienda horregatik guztiagatik muga ekonomiko eta legal guztien gainetik

gracias señora presidenta lehendakari señores consejeros señorías buenos días a todos señora ubera efectivamente compartimos todos o partimos de la base
de que efectivamente en los últimos diez años la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público se puede fijar en torno al quince por ciento

en solamente diez años de pérdida de capacidad o poder adquisitivo para todos los trabajadores del sector público

para los trabajadores por cuenta ajena y para los autónomos en muchos casos ha sido no del quince por ciento sino del cien por ciento porque ha visto destruidos sus puestos de trabajo por qué digo esto sencillamente porque creo que nos tenemos que trasladar a un momento de crisis económica y de recesión

en el que efectivamente se recaudaba mucho menos dinero del que se recauda ahora y era necesario hacer una serie de ajustes severos y serios para eliminar todo el gasto público porque no se podía mantener la administración a la que estábamos acostumbrados antes de la crisis hace diez años se recaudaba un treinta y tres por ciento menos de lo que se recauda ahora si comparamos los presupuestos del dos mil nueve con los que se van a aprobar para el dos mil dieciocho aproximadamente un treinta y tres por ciento menos de recaudación existía en aquel momento

hace cinco años ya se había empezado a recuperar y se recaudaba ya no un treinta y tres por ciento menos sino un veintidós por ciento menos es decir la situación era

y todos los grupos que están presentes en esta cámara excepto podemos que en aquel momento no existía como grupo político apoyaron esas medidas necesarias bien como parte de los gobiernos o bien mediante los pactos presupuestarios que se hicieron en los distintos legislativos para poner en marcha y para sustentar estas medidas así

y los gobiernos del partido socialista del partido nacionalista vasco del partido popular e incluso los suyos de bildu

medidas legislativas que planteaban los gobiernos del partido popular en madrid y efectivamente el recorte de la paga extra la prohibición de hacer aportaciones a las epsv los recortes en días libres los moscosos

aplicadas porque así lo exigía la ley por todos los grupos de esta cámara insisto excepto podemos la realidad es que no había dinero no se recaudaba

posiblemente los que más lo sufrieron en ese momento fueron los trabajadores del sector público hoy las cosas parecen que van mejor tenemos un crecimiento que supera la media de la unión europea

históricos y las cosas ahora deben revertirse parte de todos aquellos recortes y ajustes que se hicieron la paga extra las jornadas laborales la recuperación de los días libres etcétera eso se han revertido el del cinco por ciento todavía no

se pidió un esfuerzo a los trabajadores del sector público ellos lo hicieron y ahora tenemos que tender a recuperarlos hasta ahí creo que estamos todos los grupos que han intervenido de acuerdo que esa es la realidad de cómo se hizo pero usted nos pivota su discurso señora ubera

de madrid es una forma de llamarlo yo le diría que el gobierno está cumpliendo el marco legislativo actual cumple las leyes eso

poner un tono bastante despectivo sobre todo cuando lo que está proponiendo es que se salte la ley en las medidas

dentro de los límites que marca la ley en los incrementos de los salarios públicos no tiene otra forma de verlo

y en esas estamos y en esas tenemos que estar todos de acuerdo y al gobierno no se le puede exigir que se salte el marco normativo tampoco me parece muy lógica la postura del gobierno y el partido que lo sustenta el partido nacionalista

y en realidad sabemos que parte no la señora larrauri nos ha hecho referencia a las aportaciones a itzarri efectivamente si

hacerlo hubo un momento en que se levantó esa prohibición no se hizo

ahora se van a hacer por qué no se hace el total de lo que autoriza la ley de los presupuestos del proyecto de ley de los presupuestos del dos mil dieciocho no

y el resto lo dejamos para la negociación colectiva si era un derecho que ya tenían adquiridos los trabajadores

para la negociación sino devolverles ese derecho íntegro y empezar a hablar

cuál es la situación entonces pues que no podemos incrementar los salarios de los trabajadores por encima de los límites legales los límites legales los van a marcar los presupuestos generales

yo les voy a pedir a todos los grupos que apoyen cuando se presenten los presupuestos generales del estado para que en ese aspecto concreto puedan ser efectivas las medidas que este gobierno nos está proponiendo

no habrá un incremento del uno coma cinco por ciento para los salarios del sector público porque la ley no nos lo va a permitir y entonces culparemos a madrid de qué malo es madrid cuando tenemos la oportunidad de aprobar esos presupuestos allí

que el argumento que usted nos da señora larrauri pero es que existe otra posibilidad si tenemos limitado el incremento de los salarios a ese hipotético

es la pérdida de la capacidad de gasto que tienen los trabajadores del sector público lo que sí que podemos hacer para que esa capacidad aumente es bajarles los impuestos señora larrauri

la recaudación está creciendo el incremento de recaudación de los últimos cinco años en el irpf ha sido del veintidós coma tres por ciento por lo tanto

sin tener que incrementar su salario bruto puedan tranquilamente disponer de más dinero es decir recuperar parte o una gran parte de su poder

no se quiere plantear lo que nos dio en parte origen a la gran crisis que hemos

es que teníamos un gasto público excesivo tendremos de alguna manera que limitar ese gasto público y si no limitamos ese gasto público

públicos mejoren en sus condiciones yo no voy a poder apoyar ninguna de las dos

y eh bildu porque creo que está exhortando al gobierno a incumplir las leyes y no me parece lógico que en una cámara legislativa

las leyes que tiene obligación de cumplir y tampoco me gusta

vacía de contenido es decir yo no sé en qué va a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos con la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector público

en nada y si estamos hablando de un problema creo que nos tendremos que centrar a hablar de ese problema y las nuevas ofertas públicas de empleo en nada van a beneficiar a la capacidad adquisitiva o a la economía de las familias de todos aquellos que trabajan para el sector público vasco y exigir al gobierno

para una resolución de este parlamento es que eso va de suyo es decir no le podemos pedir al gobierno que cumpla las leyes sería como que todos les exhortáramos a que condujeran con prudencia o que se lavaran los dientes tres veces al día usted me comprenderá que

sentarse a negociar en la mesa general de la administración sí es cierto que tiene muchos problemas pero no todos son achacables al gobierno todos los sindicatos han mostrado efectivamente

comunican la inflexibilidad del gobierno para negociar pero habrá que ver sí esa mesa general se está convirtiendo en otro parlamento vasco donde lo que se discuten

lo último me parece a mí que está a la cola de las prioridades o las necesidades de los trabajadores del sector público muchas gracias

pero en este caso no he dicho eso sino que he hecho una pregunta a ver si este gobierno

por qué insiste con argumentos ante el muro con el que se encuentra bueno yo creo que sí lo sabe porque

hay que insistir y hay que no solo hacer oposición en el parlamento sino también en las calles hay que insistir en estas cuestiones porque si no lo que está claro es que

y las administraciones públicas serían de mínimos y serían un erial si los gobiernos atienden como pretenden atender constantemente todos

a los planteamientos ideológicos hegemónicos y mayoritarios en la europa en la que vivimos eso es

convencido nosotros no pretendemos aquí sustituir el papel de los sindicatos señora castelo yo creo que usted lo sabe y si no

esto es un parlamento y estamos hablando de la función pública en el caso de la función pública de la comunidad autónoma por así decirlo o por hacer una

y el gobierno es el ejecutivo y este parlamento una de sus funciones es la de control a ese ejecutivo a esa patronal de la función pública por lo tanto nosotros traeremos a esta cámara o en este caso grupo proponente los grupos que los consideran

en nuestra iniciativa está claro que no pretendemos sustituir lo que los sindicatos planteen en la mesa

lo que ponemos en nuestra iniciativa seguramente a los sindicatos les parece absolutamente insuficiente ya pondrán ellos en la mesa ya han puesto en la mesa lo que ellos consideran

oportuno por lo tanto nosotros no pretendemos jugar el papel de los sindicatos pero sí que es papel de los partidos políticos hablar de estas cuestiones y marcar posiciones o como creemos que se tiene que hacer las políticas a este respecto y por lo tanto nosotros en este caso le décimos al gobierno como nos parece

del sector público nosotros presentamos tres propuestas concretas

estoy también convencido de ello me explicará usted porqué pero entre otras cosas marcar una hoja de ruta para recuperar el poder adquisitivo sin marcar nada más

pues no es saltarse la ley no creo que marcar hojas de rutas ni pedir que se cumpla

sea inconstitucional y nosotros no es que queramos presentar un ejecutivo que no quiere aumentar y mejorar el empleo público es que nosotros lo que constatamos en los últimos años es lo que estamos oyendo a los representantes de los trabajadores

y sí nos lleva a decir que se está debilitando el sector público y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y no solo a raíz de esos recortes de los años o a raíz de los años de la crisis que pueden ustedes echarse las culpas

y el gobierno vasco yo creo que hay cada uno tiene su cuota de responsabilidad pero es que cuando hablamos de una de las cuestiones más graves que se han planteado aquí que es la tasa de temporalidad eso no es consecuencia ni de los recortes de los últimos años

esas tasas de temporalidad elevadísimas existían y es una de las cuestiones que los sindicatos han puesto encima de la mesa y no solo desde hace tres cuatro cinco seis años

cuando hablamos de las privatizaciones o lo que ustedes suelen llamar externalizaciones

muy clarito que cuando aquí compareció la unión general de trabajadores que no creo que sea el sindicato más radical del mundo expuso claramente

el gobierno vasco y que hay como décimos nosotros privatizaciones encubiertas es verdad que aquí no se hacen

basto como hemos conocido por parte del partido popular en algunos territorios del estado privatizaciones de corte

y cuando se externalizan servicios de la administración pública

y en el tiempo de manera sostenida

un beneficio y que tienen a los trabajadores en peores condiciones y con problemas con problemas que luego

conociendo en la alta tasa de conflictividad pues nosotros décimos que hay privatizaciones y eso nos aborda y no es ni

a la administración pública por lo tanto nosotros ya termino planteamos tres cosas que yo creo que son legales y asumibles y el gobierno a través de los grupos que lo apoya presenta una enmienda que yo digo que es vacía de contenido no digo que es que sea insuficiente es que es vacía de contenido porque lo que está en esa enmienda

en esto coincido con el señor ruiz de arbulo es que se le está pidiendo en su enmienda al gobierno que cumpla lo lógico que tiene que cumplir un gobierno y lo que está obligado a cumplir
por lo tanto eso nos lo podemos ahorrar eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

si mi enmienda está incorporada en la suya y la mía está vacía de contenido la suya como por lo menos tiene una parte también vacía de contenido en fin a veces los argumentos nos llevan a donde

hay algunas cuestiones que no son aceptables de lo que ustedes proponen y sí que es cierto

y en su primer punto dicen a dónde debe de llegar como mínimo la propuesta

con las posturas de sindicatos y de patronal en este caso de la administración quien tenga que determinarlo no este parlamento y deberá de tener muy en cuenta el límite legal porque en otros sitios donde ustedes gobiernan tienen en cuenta el límite legal porque la ley está para

el respeto al marco legal es el que hay por eso la enmienda nuestra sí que

solicitar o instar al gobierno dentro de la buena fe de la negociación colectiva en cuanto al tema de ope que

solventen el problema de la interinidad y en el relevo generacional y por otro lado los incrementos retributivos se haga dentro del cumplimiento de la ley que igual en este momento y con la tesitura que tenemos no es banal y dentro otras de las propuestas lo que vienen a decir es sáltese usted a la torera

y negocie con los sindicatos la recuperación total de lo perdido por cierto recuperación total que algunos dan por hecho que es el quince por ciento más o menos no sé cuándo se habla del más menos y que hubo sindicatos que en la propia comparecencia nos dijeron que desconocían cuál era realmente

era que hiciese un cálculo de cuánto podía haber sido porque sí que es cierto que en el año dos mil diez no se aplicó de forma lineal ese cinco por ciento ni afectó

a todos los trabajadores y la cuestión es que aquí siempre intentamos llevar y últimamente se está viendo en todos los asuntos que llevamos en este pleno que acaba saliendo la fiscalidad

en ese tema sino en garantizar unos recursos económicos a la administración al sector público porque para nosotros

de igualdad y de solidaridad que igual al partido popular le interesa menos pero que a nosotros

de nuestras políticas y la verdad yo

como el portavoz de podemos que los sindicatos tienen mala prensa en función pública o que se les ridiculiza bueno me parece que se les hace flaco favor ellos defienden los derechos

en el sector público si no hay acuerdo hay subida porque se aplica

también de actuar pero cuando se nos comenta el tema de defender los derechos de los trabajadores hay una cosa que elkarrekin podemos tiene que empezar a aprender ya no es una cuestión de ponerse en la pancarta ustedes ya están en la plaza de toros ya están ustedes en la arena del juego y tenemos capacidad las votaciones en distintos ámbitos en los que están y le comento y le hago que haga usted que mire para madrid en el parlamento en el congreso de los diputados para modificar una ley fundamental para

el equilibrio de las partes en la negociación colectiva sí ya sé que usted está de acuerdo lo que pasa es que lo juntan con otras posturas maximalistas de su ideario político y cuando se tiene que llegar a un acuerdo a veces hay que ser consciente de que hay que dejar parte de lo que es su ideario para concitar un acuerdo que beneficie a la ciudadanía

de eso el partido socialista de lo que es una gestión responsable y un acuerdo responsable para beneficio

señor ruiz de arbulo usted habla de las aportaciones a itzarri

el consejero se lo ha vuelto a explicar recientemente que para retomar esas aportaciones había dos límites

y otro que estuvieran suscritas antes del treinta y uno de diciembre de dos mil once con lo cual uno de los requisitos no se cumplía hasta ahora que era el incremento de la masa salarial ahora se pueden retomar con lo cual bueno pues usted ya lo sabía no haga trampas no enrede los datos

dentro del marco legal y presupuestario vigente señora ubera lo sabe los sabe usted

de verdad tengo me hago una pregunta o bueno realmente tengo la respuesta

las condiciones laborales de los y las empleadas públicas o han venido exclusivamente a criticar la actuación del gobierno

con la segunda me quedo sin duda con la segunda opción únicamente han venido a poner entredicho la actuación de gobierno no han venido a mejorar las condiciones laborales de los y las empleadas públicas porque si ese fuese el objetivo tienen en su mano

las pretensiones que en gran medida ustedes tienen en su iniciativa aprobando y apoyando los presupuestos vascos para dos mil dieciocho sí es la única fórmula posible y no vengan ustedes con una proposición no de ley que saben que no tiene ninguna validez es que es absurdo qué validez tendría si se aprueba esa proposición no de ley y no se aprueban los presupuestos vascos pues que

no tendría ningún valor y además es que es increíble ustedes le dicen al gobierno hágalo pero yo no lo voy a apoyar es increíble y

hoy mismo en el congreso de los diputados ustedes tienen la valentía de no apoyar la ley del cupo que junto a la ley de gobierno es uno de los pilares básicos del autogobierno vasco por favor no nos hable o no nos den lecciones a nosotros de autogobierno y además

y además cuando justifican sus no aprobaciones tanto a la ley del cupo o a la ley de presupuestos dicen justifican

cuando han gobernado y cuando gobiernan cumplen estrictamente con la legalidad que ustedes dicen española cumplen estrictamente con la ley del cupo la ley de función pública en la legislación básica

entonces por favor no nos den lecciones y compromiso político ustedes dudan del compromiso político que tienen en esos gobiernos cuando se someten a esa legislación no sé por qué escenifican

que este gobierno haga lo que ustedes no hacen cuando gobiernan o han gobernado pero en cualquier caso no se preocupen que nosotros

puedan ser aprobados y los trabajadores puedan cobrar esa subida salarial a partir del uno de enero y además vayan mejorando progresivamente sus condiciones laborales

usted nos pone una cifra de lo que han caído los salarios en el sector privado durante esos años de crisis pero es que para hacer ese cálculo lo que usted no tiene en cuenta es los millónes de puestos de trabajo que perdieron de cien a cero sus salarios y esos no entran en la encuesta son los que se mantuvieron y en cambio en el sector público se mantuvieron el noventa y muchos por cien de los puestos de trabajo que había por lo tanto el sector más castigado desde luego

la realidad del sector público que es lo que el gobierno no ha hecho muchas cosas por mejorar señor hernández nos dice usted que si seguimos así vamos a acabar teniendo unos servicios públicos que van a ser un auténtico

mire los servicios públicos que tiene españa desde que el mil novecientos setenta y ocho comenzó el sistema democrático son de los mejores de europa

es de los mejores de europa pero si nos trasladamos a la comunidad autónoma vasca los trabajadores públicos de la comunidad autónoma vasca los del gobierno vasco y especialmente los de las diputaciones forales tienen las mejores condiciones laborales de todo el sector público europeo sabe usted por qué señor hernández porque ustedes no han gobernado nunca porque si ustedes hubieran gobernado alguna vez y hubieran aplicado las políticas que nos están predicando todos los días que quieren llevar a cabo

serían un auténtico erial y los servicios públicos dejarían de prestarse porque esas políticas públicas no conducen a nada bueno y si no

insisto en que la temporalidad lo hemos comentado antes es un asunto que no tiene que ver nada con la proposición no de ley que estamos discutiendo hoy y que por lo tanto será

en otro tipo de iniciativas en otro tipo de debates o incluso en la comisión en un monográfico al respecto porque es un problema que no tiene nada que ver

causa alguna en los recortes o en los ajustes aplicados por los diferentes gobiernos ni de esta comunidad ni de madrid

sino a una política de función pública que se ha llevado por los últimos gobiernos vascos y ese es un debate que tendríamos que discutir después

me vuelve a sacar el asunto de las epsv sí ya sabemos que

la masa salarial se podía haber incrementado antes o en los momentos de crisis haberse reducido por otro sitio que es lo que hicieron el resto de las administraciones públicas vascas que es lo único que no hizo el gobierno vasco de ahí que seamos los últimos en recuperar la paga extra y los últimos en tener las aportaciones

elegante una vez que se han conseguido las condiciones necesarias para volver a hacer las aportaciones guardarme el cero coma cinco por ciento de aportaciones para negociarlo con los sindicatos cuando era algo que ya era un derecho adquirido por parte

esa es una de las artimañas que utiliza el gobierno muy lícitas y que están en su mano pero es lógico que con ese tipo de argumentos y ese tipo

que se hacen con los derechos de los trabajadores públicos a la larga el ambiente de la mesa general de la negociación sea absoluta y totalmente irrespirable termino simplemente para explicar señor hernández la posición de nuestro grupo el solicitar que desde el uno de enero el uno coma cinco por ciento previsto en los presupuestos del gobierno vasco a los trabajadores públicos el incremento salarial del uno coma cinco por ciento desde principio de enero independientemente de lo que ocurra con los presupuestos generales del estado

que si no hay presupuestos en madrid habría que solicitar a los trabajadores públicos que devuelvan esa cantidad de dinero eso es una potestad que tiene el gobierno pero creo que

y de esa manera poder incrementar los salarios públicos también en nuestra comunidad autónoma vasca pero si a ese uno coma cinco por ciento que ustedes están pidiendo que se abone desde ya

una cláusula que además añada el ipc que exista en dos mil dieciocho nos estamos saltando los límites legales por eso simplemente yo le he dicho que entiendo que no es una posición que esté dentro de la legalidad y por eso por lo mismo que le he explicado a la señora larrauri porque están vacías de contenido no vamos a apoyar ninguna de las dos propuestas muchas gracias

esta iniciativa de elkarrekin podemos surge después de la preocupación por la respuesta del lehendakari en la interpelación del pasado veinte de octubre

a las necesidades de las mujeres en euskadi que cada día viven situaciones de desigualdad discriminación y enfrentan violencias machistas por el simple hecho de ser mujeres

estamos de acuerdo también con las enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas socialistas y popular y agradecemos el respaldo de la señora etxebarrieta a esta iniciativa nosotras queremos que sigan avanzando

en conseguir una mayor y más eficiente gestión de los recursos para la igualdad

pero a la vista de lo que estamos viendo se confirma nuestra preocupación del pasado veinte de octubre el presupuesto total

un cero coma once por ciento del total del presupuesto según el informe del propio gobierno

en su conjunto cada vez está más preocupada y ocupada en revertir esta injusticia histórica la ciudadanía con las aportaciones históricas imprescindibles en la teoría

ha integrado el principio de igualdad de mujeres y hombres entre sus aspiraciones para construir

más justa democrática igualitaria y solidaria es necesario

para dar pasos más decididos hacia la igualdad real y efectiva y hacia una euskadi

lo dijimos el pasado diez de junio lo reiteramos en octubre también en las comparecencias sobre presupuestos y hoy volvemos a insistir porque en elkarrekin podemos

se ubiquen en el lugar de prioridad que les corresponde en la agenda política del gobierno y de este parlamento y vamos a seguir trabajando e insistiendo para que así sea

que estas tienen relación directa y se retroalimentan en consecuencia defendemos que invertir en políticas de igualdad es invertir en la erradicación de las violencias machistas y por consiguiente invertir para erradicar las violencias es invertir en igualdad la desigualdad es

y estas a su vez refuerzan la desigualdad y la discriminación son un obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos y los casos más graves y mediáticos

cada agresión es una advertencia para todas es un mensaje claro si te sales de los mandatos sociales o de género puedes ser agredida los avances en la igualdad de oportunidades no discriminación y ejercicio real de derechos por parte de las mujeres son incuestionables reconocemos todos los avances logrados pero no son lo suficiente se los debemos además todos estos avances en primer lugar

sin ellas no estaríamos hoy aquí no tendríamos los derechos que hemos conseguido hasta ahora

que algunas políticas han sido importantes para sensibilizar y visibilizar lo reconocemos valoramos el compromiso de tantas personas que desde las instituciones con recursos más bien escasos vienen haciendo esfuerzos y políticas pero necesitamos más es evidente que persiste una situación de desigualdad estructural de mujeres y hombres sustentada por un sistema patriarcal que ubica el lugar de subordinación a las primeras

en todas las esferas de la vida las cifras de desempleo precariedad laboral uso del tiempo participación política o cultural y los datos

según datos publicados por emakunde nada sospechosa en dos mil dieciséis la tasa de ocupación de las mujeres un cuarenta y cuatro por ciento frente al cincuenta y cuatro por ciento de los hombres

a tiempo parcial las mujeres son el setenta y cinco por ciento de las personas que trabajan sin contrato las mujeres en euskadi de media tienen un salario un veinticinco por ciento inferior al de los hombres las mujeres son el noventa y cinco por ciento de los complementos a la rgi por familia monoparental el noventa y uno por ciento de las rgi para completar pensiones por viudedad son solicitadas por mujeres

siguen siendo ocupadas por los hombres en cuanto a las violencias machistas emakunde estima

en el hogar considerando que hay muchas mujeres que deciden no denunciar son la punta del iceberg al no reflejar la realidad completa a las violencias machistas en el año dos mil dieciséis

la más alta desde el dos mil dos tres mil quinientos treinta y nueve llamadas recibidas al teléfono de atención en lo que vamos del dos mil diecisiete cuatro mil quinientos diecinueve mujeres han denunciado violencias machistas por parte de sus parejas o ex parejas hay

cincuenta y dos mujeres llevan escolta son datos que ponen los pelos de punta

sigo porque es que no podemos dejar de enumerarlas porque de verdad que es horrible todo lo que está pasando aquí en euskadi

judicial en euskadi el primer trimestre del año crecieron un ocho coma uno por ciento las denuncias por violencia machista de la pareja o ex pareja

además estamos asistiendo a un creciente número de gravísimos episodios de violencia hacia a las mujeres los feminicidios la trata con fines de explotación

son una realidad cotidiana y persistente el aumento de denuncias se puede

social y porque cada vez tenemos más claro las mujeres que no es no en este caso reconocemos el trabajo de las instituciones y celebramos el aumento de denuncias

para sensibilizar y concienciar también para hacer una intervención integral de prevención detección precoz atención protección y reparación

multidimensional y para los problemas estructurales no podemos ofrecer soluciones puntuales para esto es urgente e imprescindible que todo el gobierno vasco

estables y adecuados queremos una euskadi igualitaria solidaria justa libre de violencias machistas y estamos convencidas de que la mejor estrategia para la prevención de las violencias

en absolutamente todos los ámbitos de la vida a la vista del programa del gobierno de los presupuestos del tratamiento o mejor dicho de la omisión

erradicación de las violencias machistas en algunos departamentos en algunos planes en las diferentes instancias iniciativas comisiones etcétera desde elkarrekin podemos consideramos que esta vulneración sistemática de los derechos de la mitad de la población no tiene lugar o no tiene el lugar de prioridad que le corresponde

organismo emakunde cuyo presupuesto en dos mil diecisiete es más que anecdótico lo que conlleva a unas políticas sectoriales insuficientes en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas estamos lejos

en las comparecencias en las que hemos preguntado sobre las partidas específicas en cada departamento y organismo pocas respuestas han sido satisfactorias el dato más optimista lo ha facilitado la propia directora del instituto vasco de la mujer que afirma que la inversión en materia de igualdad del gobierno

un cero coma once por ciento del total del presupuesto según el informe sobre presupuestos del gobierno repito un cero coma once por ciento

este es según el propio gobierno vasco el grueso del presupuesto para acciones específicas de igualdad y erradicación de las violencias machistas el discurso del gobierno las expresiones de prioridad no se corresponden en absoluto

en la asignación y distribución de los recursos es donde podemos comprobar realmente cuál es la prioridad que le dan a esta grave vulneración de los derechos de todas las mujeres en euskadi

con las que hemos intentado por activa y por pasiva que se aborde con seriedad este problema en esta cámara y en este gobierno esta iniciativa que presentamos hoy aquí es una reivindicación de las mujeres y del movimiento feminista y un paso más a una verdadera incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas

que el cien por ciento del presupuesto del gobierno vasco presente un impacto de género positivo que a día de hoy no lo presenta por ello es necesario trabajar todo el año es necesario que el informe aislado

no se termine convirtiendo en un mero trámite que es lo que parece que está pasando hasta ahora en el que se enumeran programas presupuestarios vinculados sin realizar una valoración en profundidad del impacto de los presupuestos en la consecución del objetivo de igualdad en la moción que registramos el veintitrés de octubre instábamos al gobierno a aumentar los recursos a comprometerse

de igualdad y erradicación de violencias machistas aumentara de forma progresiva hasta alcanzar

en dos mil veinte creemos que no es una cifra como para no tenerla en cuenta y garantizar sobre todo garantizar que el cien por ciento del presupuesto del gobierno vasco

nos parece que estos tres puntos no entendemos cómo no pueden ser aprobados por toda esta cámara no entendemos cuál es el papel del psoe en todo esto

eskerrik asko señora etxebarrieta por confiar y apostar por erradicar las violencias machistas y por seguir trabajando

bozketan decía que yo lamento profundamente que hoy

unánime entre todos los partidos en relación a dar soluciones y dar problemas a la lacra de la violencia de género sobre todo a dos días

que se celebra este sábado veinticinco de noviembre lamento profundamente esa foto cuando fue posible alcanzar un acuerdo el pasado veintitrés de febrero en relación a esta cuestión y ese acuerdo supuso un avance entendíamos que hoy a raíz de la iniciativa de podemos pues se podía lograr un avance sí creemos que la iniciativa y la enmienda transacción suscrita finalmente entre el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular

entre otras cuestiones porque va a poner deberes a este ejecutivo al gobierno vasco

de las diferentes iniciativas que hemos debatido en esta cámara en el primer periodo de sesiones en relación a esta cuestión y que además conseguimos que

la remisión del proyecto de ley unos meses en relación a la previsión inicial del calendario legislativo aprobado por el gobierno la previsión inicial era del tercer cuatrimestre de remitir el proyecto de ley para la eliminación de las violencias contra la mujeres

y en el acuerdo que hemos suscrito finalmente hemos conseguido el proyecto de ley se remita antes de la finalización del primer periodo de sesiones decía que fue posible y ha sido posible una reflexión a nivel estatal y un acuerdo

podemos de forma bastante incomprensible porque además en todos los trabajos que se han desarrollado y que he tenido oportunidad de repasar estos días y al hilo del debate que hoy

de un acuerdo en el que además trabajó trabajó de forma concienzuda como el resto de los grupos con representación parlamentaria

constituida al efecto en la comisión de igualdad en el congreso de los diputados creo que he dicho informe realiza un diagnóstico muy claro sobre la situación de la violencia de género creo que además

a este problema a este problema estructural además como lo ha calificado la señora arana y además

medidas medidas que comprenden distintas actuaciones en el ámbito de la asistencia protección y apoyo a las víctimas

en un compendio de doscientos trece medidas que además también no solo incumben al ámbito estatal sino al ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamientos se hace referencia a varios ejes que creo que son los importantes y que además van en consonancia también con las líneas

presentada a esta iniciativa como son la sensibilización prevención mejora de la respuesta institucional

asistencia y protección a los menores impulso de la formación de los agentes seguimiento estadístico recomendaciones a las diferentes administraciones públicas en la que están no solo

y además con un compromiso presupuestario de desarrollar actuaciones por un importe

cinco años con un compromiso de doscientos millónes en los próximos presupuestos que ya adquirió además el otro día claramente el presidente del gobierno mariano rajoy en la respuesta que dio a una pregunta formulada en la sesión correspondiente del congreso de los diputados también se ha hablado de visualización y atención de otras formas de violencia de género el compromiso económico al que acabo de hacer referencia una comisión específica para seguimiento de este pacto y ya

y que se ha convocado la correspondiente conferencia sectorial de las comunidades autónomas

en materia de violencia de género y poniendo deberes expresos al gobierno que es lo que ha tratado el partido popular de hacer

los grupos a los que agradezco también el esfuerzo realizado y al propio gobierno pues se adquiere el compromiso como decía de remitir

con carácter prioritario como ya además lo acordamos así en una iniciativa el veintitrés de febrero del dos mil diecisiete por eso no entiendo que los grupos eh bildu podemos eh bildu y podemos se desmarquen en esta ocasión de este acuerdo

iniciativa y me voy a referir sobre todo a la enmienda de transacción suscrita entre ustedes en relación

hablan de cuarenta y seis millónes para políticas sectoriales nosotros estamos a favor de que se incremente el presupuesto lo recoge la enmienda transacción acordada que se sigan fomentando

y apoyo a las víctimas de violencia de género ya lo recoge la enmienda de transacción hombre a mí me parece un tanto precipitado y no me parece de demasiado rigor

cuando se está avanzando también en el seno de la comisión correspondiente

de todas las actuaciones en materia de violencia de género que ahora

con cantidades concretas que no sabemos a qué obedecen porque cuando

aprobado por inmensa mayoría del congreso de los diputados en el que se ha desmarcado podemos finalmente se habla de consignaciones presupuestarias esas consignaciones presupuestarias vienen fruto de unos estudios

que se sabe el dinero que van a costar pero ustedes aquí nos hablan de cifras

de dónde ha sacado esa cifra y nos habla de incrementar el presupuesto un uno por ciento que también nos dirá

cifras absolutamente arbitrarias que usted tendrá que decir en base a qué las ha puesto en su iniciativa original que finalmente también es la iniciativa en la enmienda de transacción suscrita por eh bildu creo que frente a esta propuesta que no es

los dos grupos que apoyan al gobierno pnv y partido socialista y partido popular akordio batere heldu garela eta nik uste dut akordio hau errealista dela alde batetik

eta epe zehatz batekin por lo tanto creo que el compromiso que hemos adquirido

son compromisos que sin duda suponen un avance en relación a una gestión más eficiente

reforzar los programas de apoyo a las víctimas de violencia machista en los ámbitos de sensibilización prevención y atención y prevención y por otra parte

adquirido el gobierno un compromiso especifico en el calendario legislativo

hemos conseguido que se adquiera realmente ese compromiso

por lo tanto agradecer a los partidos que han firmado este acuerdo e instar a los partidos de eh bildu y podemos

que reflexionen su posición porque creemos que no va en consonancia con los objetivos que persigue inicialmente la iniciativa que presentó

en enseñanza predominio de los chicos en los programas de cualificación profesional inicial participación limitada de los jóvenes en la formación profesional

formación profesional de grado superior la segregación se mantiene enseñanza universitaria se mantiene también la segregación trabajo productivo mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo cincuenta y dos coma dos por ciento evolución positiva tasa

las mujeres presentan tasas de actividad inferiores a los hombres

más aún a partir de cuarenta y cinco años tasa de paro de mujeres del quince coma uno por ciento mayor número de contratos de limpieza de oficinas hoteles

las mujeres conforman el noventa y cinco coma dos del empleo total en la rama de empleada de hogar las mujeres presentan con más frecuencia trabajos temporales el setenta y siete coma cinco por ciento del total de la población ocupada

lo conforman las mujeres trabajo reproductivo prestaciones por maternidad las mujeres predominio en su utilización noventa y cuatro coma siete por ciento

lenta cuidados a familiares excedencias solicitadas por mujeres han crecido las mujeres que trabajan en el mercado laboral dedican cuatro coma cinco horas diarias

uno coma seis horas diarias recursos económicos sin rentas o con ingresos

se encuentran el treinta y tres coma cuatro por ciento de las mujeres de la comunidad autónoma de euskadi con más de dieciocho años frente al dieciocho coma ocho por ciento y podría seguir mucho más

hacia las mujeres desde el punto de vista de violencia patriarcal violencia machista sino que estamos hablando de violencia económica etcétera

qué deberes amaitzeko feminismotik

sí muchas gracias presidenta hoy vamos hablar

machista los socialistas creemos que machismo y democracia son incompatibles

siempre ha tenido como eje central de sus políticas la lucha contra la violencia de género y lo ha venido demostrando

tanto en el gobierno de la nación como en los gobiernos autonómicos y locales en lo que va de año llevamos cuarenta mujeres asesinadas víctimas de violencia machista ocho menores asesinados veintitrés huérfanos desde enero del dos mil tres hasta noviembre del dos mil diecisiete

o análogas novecientos doce mujeres solo un veintiséis coma cuatro por ciento de las víctimas mortales había presentado denuncia pero no se trata

es como digo una lacerante realidad que mientras existe impide que se desarrolle nuestro proyecto de igualdad plena y esa la de la igualdad es nuestra bandera la bandera que representa a la izquierda que representa a los socialistas y gracias al empeño socialista ha pasado a ser un asunto de estado porque es cuestión de estado garantizar un país de hombres y mujeres totalmente por eso defendimos que era y es tan necesario un pacto contra la violencia de género el origen del pacto de estado es a su vez una proposición no de ley del psoe presentada en su día en el congreso de los diputados

que se necesitaba un compromiso real firme y efectivo de todos los partidos gobiernos administraciones entidades y profesionales

contra la violencia de género este pacto tiene una extraordinaria importancia

arrastrar a un pp que tampoco ha avanzado en esta materia en los seis últimos años nos toca recuperar el tiempo perdido y seguir

al que en su nacimiento hace un par de meses sin embargo no le faltó el postureo de los habituales de aquellos que tienen tanta dificultad en reconocer el valor del acuerdo no lo entendió nadie no lo entendieron desde luego los progresistas a quienes dicen representar ni las mujeres

a pesar de todo ha echado a andar este pacto de estado contra la violencia de género

para avanzar y un acuerdo de mínimos no obstante este arranque está siendo lento por parte del gobierno de españa ayer margarita robles reclamaba

son víctimas de violencia machista no pueden resistir un minuto más indicó que han pasado dos meses desde que se aprobó

el pacto y el gobierno de españa no ha aprobado ni una sola medida

para el desarrollo del pacto contra la violencia de género se pongan en marcha y advirtió que si el gobierno no lo hace el psoe presentarán

legislativas necesarias desde el año dos mil once

ha propuesto para luchar contra la violencia machista pero no nos hemos rendido porque no podíamos dejar sin protección a las mujeres los socialistas hemos puesto de manifiesto que vamos a ser absolutamente exigentes en el cumplimiento del pacto de estado dentro del pacto entre las doscientos medidas

destacamos la devolución de las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia de género como primera instancia de prevención y los correspondientes recursos económicos

y establece un sistema de acompañamiento y ayuda a la toma de decisiones con el fin de que la administración local recupere competencias y pueda actuar en la promoción de la igualdad

y hay que hacerlo cuanto antes también se procede

los organismos habilitados para la creación de la condición de víctima dejando de condicionar esta acreditación al hecho de tener una orden de protección esta medida atiende a las necesidades de extender

de género el derecho a acceder a los servicios sociales de atención multidisciplinar de emergencia de apoyo de acogida recuperación integral por eso los socialistas vamos a seguir batallando por buscar soluciones a las víctimas de violencia de género en españa con este pacto en euskadi con la ley a la que nos hemos comprometido desde el gobierno vasco creemos que debemos profundizar en la igualdad también en el ámbito económico

en lo que debe atajar su mayor precariedad la brecha salarial los impedimentos para su desarrollo profesional la conciliación

estando muy presente hay que volver a colocar el principio de la igualdad en el discurso político y la violencia de género entre sus prioridades

más vulnerable de nuestra sociedad y el más desprotegido y perjudicado con tantas reformas impuestas por la reforma laboral que le sigue haciendo dependientes

por las tasas judiciales limitando el acceso de defensa a quienes parten de una situación de inseguridad por la reforma local que desmanteló los servicios de apoyo a las víctimas y que hay que volver a recuperar en breve

que sigue depositando en las mujeres el mayor peso de las atenciones en el hogar aumentando su dependencia económica y limitando sus posibilidades de tener una vida propia o por la eliminación de una asignatura la llamemos como la queramos llamar que sea clave en la prevención de la violencia de género no podemos

de formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas en valores como el respeto y la dignidad de las personas y la igualdad

la ley integral del dos mil cuatro impulsada por el gobierno socialista supuso un hito un antes y un después y una apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia de género

integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género pero falta todavía mucho camino por recorrer desde entonces se han conseguido cambiar inercias y conciencias

de cada cual ante estas agresiones ha pasado más de una década donde podemos dividir con nitidez dos etapas muy diferentes entre sus siete primeros años de avances

los siete de avances fueron de la mano de un gobierno socialista decidido los seis de retroceso han ido de la mano del grupo popular que ha recortado el presupuesto destinado a violencias de género en la anterior legislatura se recortó un treinta y tres por ciento

en igualdad y en políticas de violencia de género se recortó un veintidós por ciento aquí no hubo recortes presupuestarios precisamente porque el partido socialista puso encima de la mesa para apoyar los presupuestos en la anterior legislatura

de violencia de género han faltado políticas de igualdad y han suprimido asignaturas como educación para la ciudadanía y ello ha contribuido a

el veintisiete coma cuatro por ciento de los jóvenes de este país consideran que es normal

en el ámbito de las parejas cuando no es normal y estamos hablando de jóvenes ahora constatamos que no estamos logrando la eficacia que habíamos deseado en los jóvenes es preciso que niños y niñas adolescentes y jóvenes interioricen la igualdad como valor esencial para la convivencia entre

y en materia de violencia de género el partido socialista y los socialistas vascos estaremos siempre

para avanzar en esta materia por eso damos valor a este acuerdo suscrito porque tenemos que recuperar tanto tiempo perdido y el partido popular quiere participar en esta tarea

para que se incorpore en el congreso de los diputados al pacto de estado y también aquí el grupo socialista está convencido de que ensanchar acuerdos y sumar

continuaremos buscando a quienes quieran convertir en realidad la igualdad plena de derechos de las mujeres y a sus hijos y a sus hijas en el congreso y aquí en euskadi con la ley a la que nos hemos comprometido y por eso apoyamos

entre el grupo nacionalista vasco los socialistas vascos y los populares vascos porque supone avanzar también aquí avanzar en una mayor eficacia en la gestión de recursos destinados a políticas

de género en los ámbitos de sensibilización prevención atención y protección y también avanzar y poner una fecha para que el proyecto de ley de erradicación de la violencia contra

pueda ser una realidad dentro del primer periodo de sesiones del año dos mil ocho yo creo que eso es avanzar aquí y el pacto de estado

como decía las instituciones tenemos una gran responsabilidad pero no somos las únicas partes implicadas en esa labor

que las leyes por sí solas no pueden transformar el cambio de valores y la transformación social

y son necesarias por supuesto este gobierno adquirió compromisos como impulsar la igualdad en el ámbito laboral erradicar la violencia contra las mujeres o impulsar la igualdad como pilar fundamental del desarrollo sostenible entre otros muchos

con el fin de erradicar la desigualdad en nuestra sociedad porque efectivamente nosotros también compartimos que el fondo de la cuestión está en la desigualdad en esta labor la financiación es un pilar importante por supuesto muy importante

la señora arana afirmaba en su moción que los veintidós millónes que destina el gobierno vasco a la igualdad suponía un cero coma cinco por ciento del presupuesto total

así se había afirmado por parte de la señora arana en la anterior interpelación y también en la moción entonces sí que me gustaría aclarar que el presupuesto del gobierno para el dos mil

por lo que los veintidós millónes sería según nuestros cálculos

cuatro veces el porcentaje que en un principio se señalaba y que se planteaba al menos en la moción inicialmente elkarrekin podemos y euskal herria bildu proponen aumentar para el dos mil dieciocho a cuarenta y seis millónes la cantidad destinada a políticas de igualdad

y que en el dos mil veinte sea el uno por ciento del presupuesto alrededor de ciento diez millónes

demasiado seria en la lucha contra la violencia machista como decía en euskera

ustedes la señora arana y la señora etxebarrieta plantean en su enmienda transaccional que el presupuesto destinado a políticas de igualdad sea del uno por ciento del presupuesto general de cara al dos mil veinte

la señora garrido ya ha planteado durante su intervención la duda que le suscitaba esta cuestión y también es compartida por este grupo sí que nos gustaría saber a qué se debe

el fijar esa cantidad como tal si está motivada en base a algún proyecto cuantificado en ese concepto o si se ha tomado

o gobierno donde se actúe de manera más eficaz o mejor en políticas de igualdad es una postura fijada por sus partidos como criterio general en relación con las políticas de igualdad es suficiente esa cantidad señora arana señora etxebarrieta

y lo que nos parece curioso es que estas mismas premisas no se cumplen ahí donde podemos gobierna o apoya de algún modo a partidos que gobiernan o ha apoyado a gobiernos porque

en esos casos no se establece el uno por ciento a la hora de financiar políticas de igualdad allí donde ustedes gobiernan o apoyan al gobierno tenemos los ejemplos de castilla la mancha del ayuntamiento de madrid del ayuntamiento de zaragoza de extremadura de nafarroa

hablamos de un cero coma diecinueve de un cero coma treinta y siete en madrid efectivamente pero el resto son cero coma once cero coma diez cero coma siete cero coma seis cero coma siete

o allá donde podemos ha facilitado que se gobernara

no llegan al cero coma dos y teniendo en cuenta esos datos no llegan al cero coma dos que en euskadi se implementa pero no llega al cero coma cuatro que proponen ustedes para el año que viene

entonces teniendo en cuenta estos datos es acaso euskadi el lugar donde los índices de desigualdad son mayores a esos otros lugares yo diría que no

las políticas del gobierno vasco están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible dos mil treinta fijados por naciones unidas y euskadi ha logrado el quinto puesto en el índice de igualdad de género europeo por detrás de suecia de finlandia de dinamarca y países bajos y por delante de veinticuatro países de la unión el gobierno vasco aspira a ocupar el cuarto puesto en el índice europeo de igualdad el estudio de eustat señalaba efectivamente que en el dos mil dieciséis

creemos que esta es una prueba más de que las políticas públicas

y muchos proyectos muchos planes muchas actividades todas ellas dan sus frutos quedan por tanto el reto de acelerar aún más y de manera urgente el proceso hacia una igualdad real y efectiva y aun así

no porque nunca será suficiente el esfuerzo mientras una sola mujer sufra cualquier signo de violencia

a pesar de los avances y que de nuestras políticas son un referente para otras instituciones el índice se sitúa aún en los cincuenta y ocho coma cinco puntos

se encuentran a medio camino de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres sigue estando lejos el objetivo de la igualdad plena real y efectiva entre mujeres y hombres y en todas las esferas de nuestras vidas y el compromiso de este gobierno es firme

se traduzca en igualdad real y efectiva este país avanza desde la autoexigencia mostrada por las políticas públicas de igualdad con la autoevaluación y la mejora

evaluar para conocer de primera mano los efectos de las políticas públicas y poder corregir y poder afinar evaluar para dar voz a la ciudadanía y fomentar la participación social la evaluación es una herramienta de participación y transparencia un instrumento al servicio del buen gobierno y voy a dejar aquí mi intervención

señora garrido y al resto vamos a hablar por última vez del pacto de estado a ver si les queda claro los motivos políticos que justifican nuestra abstención son los siguientes se lo recuerdo por si todavía hoy alguna tiene dudas

las subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso compromiso económico de cien perdón de mil millónes a repartir entre todas las administraciones del estado

pero de momento a día de hoy todavía no hay nada por parte del gobierno ni tan siquiera el compromiso de especificidad o finalidad de las partidas presupuestarias

no queremos que el dinero que deba ser invertido en casas de acogida se utilicen subcontratas a amigotes para carreteras con lo cual estamos muy preocupadas con todo esto no se incorporan

señora garrido tampoco se permite la participación de las mujeres y colectivos feministas como lo hacen en otros organismos como la onu o el consejo de europa eso también va para usted señora sánchez

por favor qué hacemos no incorporando al movimiento feminista en los pactos de estado

un enfoque feminista que supere el marco conceptual y legislativo de la ley orgánica uno barra dos mil cuatro de medidas de protección integral contra la violencia de género necesitamos un nuevo marco contra la violencia de género necesitamos un nuevo marco de violencias machistas que no genere víctimas de primera

creo que son motivos suficientes para habernos abstenido el postureo del pp y del psoe solo tiene

presupuestos nosotras estamos pidiendo que se aumenten los recursos en temas de igualdad para erradicar las violencias machistas y el gobierno no lo aumenta vamos a hablar por si no saben qué hacer con ese dinero señora

dotar de presupuesto real a todo lo que dicen que van a hacer sin dinero porque sin dinero hay buena voluntad y palabras pero no hay política pública posible en segundo lugar poner en marcha todas esas recomendaciones que se indican en el informe sobre el impacto de género a los presupuestos

y tercero si aprobamos esta moción nuestro grupo parlamentario no tiene ningún problema en dar el primer paso y asumir el liderazgo que debe ejercer el propio gobierno y no lo está haciendo

con medidas para todas y para todos y cada uno de los departamentos y organismos

ya sabe lo que puede hacer puede aprobarlo y seguimos trabajando señora garrido

iniciativas pero realmente piensan ustedes que esto es suficiente que lo que van a aprobar ustedes es suficiente si eso ya estaba aprobado

cera al gobierno que bien que lo están haciendo todo perfecto vamos a seguir trabajando pues sigan trabajando pero háganlo las leyes por sí solas no resuelven problemas

son papel para un cajón seguimos señora sánchez

una señora la señora sánchez que es incapaz de contestarme ni tan siquiera la propuesta que le hacemos

y usted ni tan siquiera se ha sentado a dialogar ni tan siquiera ha venido a mi mesa a decirme oye señora arana podemos llegar a un acuerdo

qué posibilidad tiene esta iniciativa que usted está presentado es que ni se dignado en contestarme

me sorprende y me deja estupefacta que el psoe esté respondiendo así a una llamada del movimiento feminista si este es

espero que no de verdad que a mí me deja un poco descompuesta con respecto a lo que dijo

principalmente del gobierno principalmente el gobierno primero porque es urgente

segundo porque así lo establecen los convenios internacionales tercero porque ustedes en su programa de gobierno euskadi dos mil veinte once legislatura dos mil dieciséis dos mil veinte

señoras y señores del partido nacionalista vasco y de sus socios de gobierno

iniciativa dos reforzar las actuaciones de sensibilización y prevención encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres destinadas al conjunto de la sociedad y con especial incidencia

qué están haciendo me puede decir qué están haciendo tercero iniciativa incorporar medidas concretas para el resarcimiento económico y moral y el reconocimiento social de las víctimas

de resarcimiento con presupuestos insuficientes y que además a día de hoy van a ir a menos

que van a menos me quiere decir usted cómo va a llegar a realizar todo eso y por último ya termino

en los hechos el ejercicio real y efectivo de los derechos de la mitad de la población no son prioritarios para este gobierno lo siento mucho pero no son prioritarios si fuesen prioritarios ustedes estarían poniendo muchos más recursos para

estructural no es una lacra es un problema estructural que afecta a toda la sociedad educativa económica social hace poco hemos visto cómo el lehendakari estaba dando unos premios a los empresarios vascos en las que solo premiaba a hombres de verdad que no encontró ni a una sola mujer empresaria a la que premiar de verdad me lo está diciendo termino

y eso es un gran error pues demuéstrenlo cien por ciento de presupuestos con perspectiva de género

y la vida libre de violencias machistas se instalen como no puede ser de otra manera

en todas las políticas y en todos los departamentos del gobierno vasco eskerrik asko eskerrik asko arana andrea euskal talde popularrak garrido andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta bueno señora arana yo creo que el ejercicio de la política es algo más serio que lo que usted acaba de hacer en esta tribuna y por respeto

votado a la formación elkarrekin podemos que le ha posibilitado a usted tener un escaño como al resto de sus diez parlamentarios en esta cámara yo creo que es mucho más serio que el ejercicio que acaba usted de hacer en este momento

patrimonializar determinadas iniciativas de forma poco rigurosa endeble

en contra porque uno se queda fuera de acuerdos que es difícil justificar su posición precisamente porque ha traído iniciativas a la cámara para

en esta cámara hace mucho tiempo señora arana mire cuando yo entré en este parlamento hace ya unas cuantas legislaturas

en esta materia entre todas las formaciones políticas fruto de una ponencia en la que tuvimos la comparecencia de expertos de asociaciones esa participación a la que usted alude de forma sistemática la tuvimos en ese momento mujeres víctimas de violencia de género y llegamos a un acuerdo muy amplio un acuerdo que ha posibilitado que se avance en esta materia y que sin duda también podríamos recuperar muchos de esos puntos para seguir avanzando en un futuro esos son

arana repasando un poquito la hemeroteca debería de tomar

en esta cámara un acuerdo en lo que muchos grupos hicimos un claro

que muchas de ellas se han implementado y otras de ellas no me pueden decir

señora arana señora etxebarrieta qué les parece mal del acuerdo suscrito por el grupo popular por el partido nacionalista vasco partido socialista y partido popular

vamos a tener ocasión de debatir los presupuestos veremos con qué atención mirará las enmiendas del partido popular en relación con esta cuestión

necesario y algo desde luego que se ha puesto de manifiesto por parte también de colectivos esos colectivos a los que usted les gusta tanto tener en cuenta

dependencias específicas en los palacios de justicia para tener espacios propios para las víctimas de violencia de género

veremos cuál será el voto de podemos también presentaremos otras más me puede decir señores de podemos y eh bildu qué les parece mal

de los recursos en relación a las políticas destinadas a la igualdad me pueden decir señores de eh bildu y podemos qué les parece mal de que el gobierno refuerce programas en relación al apoyo a las víctimas de violencia de género me pueden decir qué les parece mal en relación a la sensibilización

atención y protección de las víctimas de violencia de género me puede decir qué les parece mal de estas cuestiones me puede decir qué le parece mal que es algo que ustedes no han introducido en su enmienda qué les parece mal de que el gobierno adelante el grabazio akatsa de erradicación

en el primer semestre en el primer periodo de sesiones del dos mil dieciocho me puede decir qué les parece mal de todos estos puntos concretos que son deberes para el gobierno en la enmienda de transacción suscrita

específicamente qué les parece mal compromisos presupuestarios me hacía referencia la señora arana

congreso de los diputados el proyecto de ley de presupuestos se van a presentar y hay un compromiso de incrementar de forma sustancial las políticas destinadas a la violencia de género yo la verdad es que cuando le veo además siguiendo con su postureo que se está riendo cuando estamos hablando de un tema tan serio de un tema tan grave

la verdad me dice mucho de la voluntad y de la intención de su iniciativa original mire hay un compromiso si ustedes están de acuerdo con esos compromisos espero que tenga una actitud constructiva en esos presupuestos en la tramitación

presupuestos postureo claro que postureo escenificación cuando podemos ha participado en todos los debates en el seno

en la comisión correspondiente y ha participado y todos esos expertos que ustedes

en llamar a los distintos agentes expertos participación de las víctimas señora arana participación de las víctimas que han

muchas de las cuales por no decir la inmensa mayoría sean recogido en ese informe en el que ustedes

se abstuvieron ustedes tendrán que explicar por qué se desmarcaron de ese informe

porque era un acuerdo de mínimos pero son las razones que les ha llevado a su grupo grabazio akatsa me quiere explicar la contradicción

el mismo acuerdo a tener una posición en el senado y a tener una posición radicalmente contraria en el congreso de los diputados

considera que en esta como en otras materias hay que avanzar hay que avanzar con medidas efectivas con medidas eficaces con medidas realistas

una plasmación presupuestaria y también a través de las enmiendas que vamos a presentar los distintos grupos a los presupuestos

a raíz de las responsabilidades que hemos tenido en el gobierno de españa por lo tanto lamento profundamente que en este tema

su compromiso llegue más allá de traernos aquí una iniciativa no hay voluntad real por parte de podemos porque como digo la política obedece a un

cuando llega la hora de adquirir compromisos de verdad en relación a todas las víctimas que ha señalado y víctimas vascas también las señora eh bildu y podemos han mirado claramente

de los diputados en ginela barkatu ez dut horretarako prestatu

que le ha metido al partido popular y a la señora garrido y luego decide invertir el tiempo en la consecución de un acuerdo con el partido popular pues

lortu duzuena deberes deberes qué deberes si ya está acordado y para nosotras no hay ninguna prisa en que se adelante tres o cuatro meses que traigan

es que se haga un buen proceso que emakunde tenga el tiempo necesario para que haya una buena participación de los movimientos feministas y asociativos y que traigan una buena propuesta y sabemos que la van a traer sabemos que hay una metodología puesta en marcha entonces

aplaudir ni aprobar es muy fácil entender nuestro no nuestro no a vuestro acuerdo porque viene a decir

más los puntos a los que hacía referencia y que yo también le he preguntado y no me ha respondido en qué

se refieren cuando dicen reforzar qué es reforzar porque yo creo no no señora garrido cada una tendrá una manera de analizar y estoy de acuerdo

es una pregunta a la que le tendríamos que haber respondido antes y creo que podría ser un punto de partida para que decidamos entre todas en qué tenemos que invertir porque sí que creemos que tenemos que invertir más

que estamos a favor de subir más del uno del dos del tres y del cuatro por ciento

hace un análisis sobre los presupuestos con perspectiva de género o las partidas concretas que

vamos a ver señora etxebarrieta he puesto de manifiesto muy claramente en mi primera

evidentemente en todo este proceso había dos periodos perfectamente diferenciados los siete primeros años de avance de la mano del partido socialista y seis años de parón y retroceso que ha habido de la mano del partido popular y lo he puesto de manifiesto porque ha sido así lógicamente y cuando se está haciendo referencia

hay que dejar muy claro cuáles son las diferentes fases

hay que seguir avanzando por eso nosotros hemos promovido que

este pacto de estado contra la violencia de género el pacto de estado contra la violencia de género trata de aprovechar

o carencias para dar respuesta y acrecentar

con más y mejores medios qué mejor avance que esto evidentemente señora arana usted lo que le molesta es la solidez del partido socialista

de género en mi primera exposición he demostrado todo lo que el partido socialista ha hecho en la lucha contra la violencia de género

le irrita porque además tiene pecado con la postura que ustedes han tomado en el pacto de estado contra la violencia de género sí señora arana sí tienen bastante pecado la abstención de podemos para el psoe significa una prueba

así como con las mujeres víctimas asimismo pone de manifiesto la irresponsabilidad

ha sido la aprobación por su partido en la comisión en el senado de este pacto y la abstención en el congreso

lo injustificable nosotros lo hemos promovido

hemos estado en la elaboración lo hemos firmado por responsabilidad de estado

no han demostrado tener en el último momento a la hora de firmarlo como también no la tuvieron a la hora de apoyar el pacto antiterrorista

que han tenido en cataluña señora arana señora etxebarria

ustedes no han explicado de donde sacaban las cifras se lo han preguntado los distintos grupos

no lo han explicado el pacto de estado contempla

en concreto y establece un presupuesto de mil millónes de euros para los próximos cinco años que habrá que ir definiendo en los presupuestos generales del estado que

aprobado ya doscientos millónes mediante un decreto a propuesta del partido socialista en el congreso de los diputados

para avanzar mientras se aprueben los presupuestos generales del estado para poder tener dinero ya para poder

al pacto de estado y por otro lado dentro de la subcomisión le recuerdo que hubo muchas comparecencias de diferentes profesionales de diferentes

y se recoge todo lo que dijeron cada uno de ellos en las comparecencias y aportaron todos estos expertos todas estas asociaciones

solicitaron o quisieron intervenir hicieron sus aportaciones dentro del informe entonces qué tiene que decir contra eso hubo aportaciones de todo tipo entonces léase el informe de la subcomisión léase todo lo que dijo todo el mundo porque participaron todos

expertos antes de la elaboración del informe luego por parte de la subcomisión y antes de ir al pleno yo entiendo que evidentemente en este

porque es completamente incongruente que ustedes no firmaran

contra la violencia de género pero ustedes tendrán que asumir las posturas que realizan ustedes desde luego lo que ustedes plantean aquí

lo que nosotros firmamos sí que avanza sí que avanza aunque no se cuantifique exactamente una cifra y ustedes lo saben y además

en la definición de la fecha para la realización de la ley de la violencia de género aquí

y por tanto nosotros vamos a apoyar esa enmienda transaccional firmada con el partido nacionalista vasco y con el partido popular porque supone un
avance en esta materia nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

en relación con los premios a los empresarios el lehendakari urkullu por supuesto es

el gobierno vasco quien decide quiénes son los premiados y el año pasado la premiada fue maría luisa galardi

retomando mi intervención de la primera parte decíamos que no hay que caer en la autocomplacencia

firmes y así se ha conseguido que euskadi haya sido pionero en muchos aspectos y no se puede negar la evidencia eso es así en mil novecientos ochenta y ocho se creó emakunde el instituto vasco de la mujer en dos mil cinco se aprobó la ley de igualdad de mujeres y hombres en euskadi una ley que declaró prioritaria la eliminación efectiva

y la adopción de las medidas necesarias para fomentar su participación en todos los ámbitos de nuestra comunidad y asimismo asumió la tarea de impulsar una acción coordinada en la materia

y cuya implementación ha sido premiada por naciones unidas una norma pionera y referente para otras que ha contribuido a consolidar una importante

que ha permitido que incluso en época de crisis el personal y el presupuesto dedicado a la igualdad se haya mantenido sin grandes retrocesos esta estructura que ha indicado especialmente en el ámbito público

cabe destacar también que desde hace varios años el gobierno vasco emite un informe de impacto de género en sus presupuestos que ha sido comentado también en el debate cuántos gobiernos

que trabajen con este instrumento qué tengan una herramienta tan potente la propia emakunde que la señora arana decía que no es sospechosa pone en valor este informe de impacto de género y el liderazgo que el departamento de hacienda en este caso que es indicativo de compromiso e incluso cuando la señora etxebarrieta durante el debate presupuestario preguntó

que era totalmente pionero que lo presentaron en europa en el instituto de la igualdad y que lo han acogido con muy buenos ojos entonces

lo que recoge y las medidas que propone implementar efectivamente que puede ser una debilidad porque hay algunas que

pero es la ruta es el objetivo a seguir

que se fija para avanzar en políticas de igualdad en este país como decía detecta deficiencias pero es que marca el camino a seguir marca hacia dónde se debe avanzar cómo mejorar y lo más importante que existe un compromiso de este gobierno para cumplirlo

acaso conocemos mayor compromiso que ese lo conocen ustedes nosotros no lo conocemos desde luego

que no hay ningún problema en que conjuntamente adoptemos los compromisos

vale pero primero se dota y después se adoptan los compromisos es lo que usted ha dicho aquí yo sé que comparto lo que decía la señora etxebarrieta efectivamente primero fijemos esos compromisos

para qué no no los compromisos están sin fijar

con las cuales el gobierno dispone es el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres dos mil dieciocho dos mil veintiuno que se encuentra en este momento en proceso de elaboración que fija

múltiples acciones para llevar a cabo otra más

y ya está no es mucho más lo que hace este gobierno tenemos hezkidetza plana

muy importante y muy significativa eso no lo podemos evitar

ongi etorri ongi etorria ematen diozutenei bienvenidas las que dais la bienvenida

aldarrikatzen dugu la guerra de yemen que empezó en dos mil quince según datos de la onu ha supuesto la devastación de infraestructuras sanitarias

de yemen una emergencia alimentaria que afecta más del ochenta por ciento de la población

del brote de cólera erradicado en aquel país que está suponiendo una crisis humanitaria sin precedentes podemos decir que la guerra de yemen tiene un origen interno puede ser pero tanto el papel de estados unidos como el papel de arabia saudí encabezando una coalición

soberano es a todas luces intolerable podemos decir que es una guerra

pero como siempre no es el islam sino que es el maldito petróleo lo decía grabazio akatsa la geografía es un arma para la guerra

no porque tenga recursos sino por suposición geoestratégica porque quiere hacer allí un oleoducto evitando el estrecho de ormuz que está controlado por su gran rival que es irán y podíamos estar hablando mucho tiempo

pero no solo por esto por esta guerra cuestionamos la venta de armas europeas españolas y también vascas a arabia saudí arabia saudí es una de las mayores y peores crueles dictadura a lo largo y ancho del mundo y está organizado por una familia real absolutista y

una dictadura que tiene miles de presos políticos y de presas políticas

en dos mil seis a cuarenta y siete personas que es conocida por el trato humillante por decirlo de una forma suave hacia las mujeres que viven en arabia

histórico del terrorismo islamista antes y ahora fuera y dentro de sus fronteras eso sí y que quede claro también es un gran sitio para invertir

acompañado de toda la corte del ibexmenos treinta y cinco para eso sí que es un buen país arabia saudí eso hay que reconocerlo

está en arabia saudí apoyada por el departamento de desarrollo económico del gobierno vasco intentando hacer negocios supuestamente en los sectores de ingeniería máquina herramienta componentes de automoción y sector de hidrocarburos

en yemen si ganan como de momento parece la guerra por estas razones cuestionamos la venta de armas europeas a arabia saudí por estas razones el parlamento europeo pidió el embargo de la venta de armas a arabia saudí y por eso reflexionamos si además de la venta de armas es ético tener relaciones políticas y tener relaciones comerciales con un país de estas características

sacar a arabia saudí de cualquier documento estratégico que está

vasca en cualquier viaje que apoye el gobierno vasco

comercio mundial de armas por desgracia se dispara año a año

material de defensa por valor aproximadamente de tres mil setecientos millónes de euros creo

es cómo no arabia saudí más de quinientos millónes de euros y había un poquito de todo porque hay aviones

y munición según el gobierno como es secreto nos tenemos que fiar de lo que nos dice o no

del país es decir seguramente según esto no podía emplearse en la intervención militar que se está haciendo en pero es que esas

en yemen y vamos a confiar más en lo que se encuentra en el terreno o en la palabra del gobierno este gobierno tan democrático y tan amigo de arabia saudí como las actas de la junta interministerial que

en el terreno como decía año a año se superan los records y euskadi también tiene por desgracia su papel se calcula que el quince por ciento de estas ventas tiene origen aquí en euskadi unos quinientos cincuenta millónes de euros hablo del conjunto de las armas

accesorios accesorios puede parecer bonito hablamos de munición

vendió por valor de ochenta y cinco millónes de euros en dos mil dieciséis líder absoluto del estado un ranking también un ranking más que encabezamos por cierto apúntenselo y un cincuenta por ciento de los mismos de esas ventas van a arabia saudí datos de la agencia tributaria no de intermón ni de greenpeace ni el informe de armas ni el centro de ni nada datos de la agencia tributaria por otra parte

aeronáutica y aeroespacial vasca que tiene también un componente civil pero que tiene también un fuerte componente

participan en consorcios europeos destinados a aviones de transporte militar

bonito también llevan ayuda humanitaria a veces pero también

del eurofighter creo que esto ya sí que no lleva ninguna carga humanitaria en ninguno de sus vuelos y este eurofighter se ha vendido a arabia saudí

por eso pensamos que no se puede financiar que no se puede colaborar que no se puede ayudar además de porque lo diga una ley aprobada por este parlamento en el año dos mil siete por que no es

empresas que desde el año dos mil nueve las que tenemos certificadas han recibido al menos diez millónes de euros en ayudas al a innovación

de munición no podía más que acordarme del puerto de bilbao porque no es que el comercio de armas en el puerto de bilbao sea una cosa reciente

sino que un bombero objetor de conciencia que se negó a colaborar en un dispositivo de carga de armamento con destino a arabia saudí consiguió ponerlo en primera plana consiguió remover las conciencias consiguió sacar a la calle a centenares de personas en euskal herria

precisamente por eso para que todo esto no dependa de la conciencia de una sola persona o de varias o de miles

de un pueblo es por lo que apelamos a un cambio en el modelo de las relaciones

de las relaciones comerciales pero también y lo volveré a decir luego no somos kamikazes en esto apostamos por la reconversión o por la conversión mejor dicho

militar vasca en una industria al servicio civil al servicio

que además de reportar beneficios sean éticos y contribuyan al desarrollo humano porque tenemos que ser coherentes

yo le decía que estábamos de acuerdo con esos grandes titulares con esas grandes líneas del gobierno vasco desarrollo humano

hasta ahí todos y todas yo creo que vamos a estar de acuerdo

no es apostar por el desarrollo humano y tampoco mucho menos por el bien común y me dirán que no hay ayudas sí las hay las que he citado y hay otras también más camufladas pero incluso si no las hubiera y como ahora que no tenemos competencia para impedir el comercio de armas se lo preguntaba el otro día al señor lehendakari una declaración

tiene un valor simbólico y un valor político de incalculable valor se lo preguntaba como decía al señor

legalidad que es lo que solemos estar acostumbrados aquí a escuchar todo es legal seguro

en duda pero todo es ético todo vale yo creo que tenemos que pensar sobre ello

nosotras y nosotros en este momento es una cosa que está recogida en el estatuto pero también proponemos convertir

para euskadi y para el mundo y por eso décimos que en esa competencia de armas trabajemos en base al tratado de comercio de armas que legalmente aunque se hayan quedado muchas cosas fuera es una herramienta muy potente otra cosa es la implementación del mismo trabajar en una normativa junto al estado español

están explícitos el documento del programa de gobierno que habla del desarrollo humano y también el documento del año dos mil dieciséis sobre coherencia

evidentemente además de solidarizarnos con la población civil de yemen exigimos al gobierno vasco romper cualquier relación política o institucional también con cualquier organismo oficial y también privado de arabia saudí así como suspender cualquier opción estratégica del gobierno vasco en arabia saudí

el viaje de esta semana a mí la verdad por mucho que sea indirectamente hay apoyo del gobierno vasco se está haciendo un viaje ahora mismo hay relaciones comerciales y probablemente haya relaciones que por escrito no las podamos tener pero que seguro que las hay

de salida y cualquier puerto vasco sea puerta de salida de cargamentos de armas con destinos a países o a países que vulneren los derechos humanos tanto en el interior de sus fronteras como fuera de las mismas arabia saudí cumple las dos condiciones y además con creces

en marcha que nos tendrían que ayudar pedimos un observatorio vasco de internacionalización de empresas y de derechos humanos si estamos ahora en el momento de revisión de la política de internacionalización del gobierno vasco creo que es el momento adecuado

ese tipo de medidas por eso pedimos también transparencia en el comercio

en madrid que las actas fueran públicas de momento no lo son y no confiamos en que lo sean por qué porque también hay un acuerdo

todo eso un acuerdo del dos mil dieciséis que se conoció en dos mil diecisiete en el cual se imposibilita que conozcamos los contenidos exactos del comercio con arabia saudí

contenidos por eso vuelvo a decir que solicitamos al gobierno vasco que cumpla la carta de justicia y solidaridad con los países empobrecidos y que no se financien por activa por pasiva por delante o por atrás ninguna empresa de la industria militar por eso el parlamento

armas a arabia saudí y a todos los países socios de su coalición

como todos aquellos casos en los que exista serio peligro de cometer graves vulneraciones del derecho internacional

derechos humanos y se está haciendo o aprovechando dichas vulneraciones y se está haciendo en nuestro nombre no eskerrik asko

el dieciséis de agosto de mil novecientos cuarenta y siete en la sala número seiscientos del palacio de justicia de núremberg comenzó el juicio contra

el gigante de acero alemán se le acusaba de haber colaborado con el ejército alemán en crímenes de guerra en su defensa

aparentemente tranquilo dijo lo siguiente nunca

por ideales políticos solo queríamos un sistema que ha funcionado bien y nos ha permitido trabajar sin obstáculos la política

y especialmente quiero dar las gracias y la bienvenida a y que son personas

aquí mientras no pueden volver a su país y están perdiendo allí a su familia gaiari helduz duela gutxi

y el negocio de la guerra se manejan bien en la oscuridad y hay un tupido velo que dificulta mucho saber lo que esconde este negocio de largos tentáculos

en los últimos dos años suman seiscientos sesenta y uno millónes de euros la lista de ventas incluye armas pequeñas munición bombas torpedos cohetes misiles

repuestos para esos aviones de fabricación española equipos electrónicos equipos de contramedida granadas de mortero munición de artillería

equipos para un sistema de vigilancia perimetral y aviones de reabastecimiento en vuelo que son esenciales para la campaña de bombardeo en yemen esto

una pequeña parte de un negocio que va

de los trescientos seis millónes de euros de exportaciones hace quince años a los cuatro mil trescientos sesenta y dos millónes de euros exportados el año pasado

está saliendo del puerto de bilbao la semana que viene llega el buque

a por su ración mensual de contenedores de armamento y el once de diciembre

y el cuatro de febrero vuelven otra vez y el veinte de febrero vuelven otra vez

y arabia saudí no es coleccionista de armas las usa parte de ese poderío está siendo utilizado en la operación

no solo en contra de la ética sino en contra de la ley y para que esto suceda son necesarias muchas colaboraciones y muchas demasiadas autoridades mirando para otro lado en enero de este año mientas el rey de españa cerraba negocios de armas en arabia el informe del grupo de experto sobre yemen del consejo de seguridad de la onu

cometidas por todas partes y denunció que la coalición saudí vulneró el derecho internacional humanitario en ataques aéreos contra viviendas mercados fábricas y hospitales

se han registrado trescientos veinticinco ataques verificados a instalaciones sanitarias escuelas mercados carreteras y otras infraestructuras

también advirtió de que siete millónes de yemeníes habitan zonas con elevado riesgo de transmisión del cólera ha servido de algo ahora estamos

en este tiempo otros trescientos centros de salud han resultado dañados

de mayo también es el informe de amnistía internacional entre otros que decía que el gobierno español no puede ni debe ser cómplice de estos crímenes

los grupos parlamentarios no deben prestar apoyo político para este tipo de operaciones y deben emprender todas las acciones a su alcance para impedir que esta operación se lleve a cabo en esas estamos en septiembre el alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos presenta su informe y dice que desde marzo de dos mil quince han muerto cinco mil ciento cuarenta y cuatro civiles

son a causa de los bombardeos de la coalición saudí por cierto saben dónde han sido entrenados los pilotos saudíes que están bombardeando yemen

se están realizando con los famosos eurofighter y saben de qué van cargados los bombarderos de misiles

que en parte se están fabricando en euskadi el seis de octubre sale el último informe sobre niños y conflictos armados de la onu que incluyen a arabia saudí y la coalición

que asesinan y mutilan a menores de edad este mes el día nueve el coordinador de asuntos humanitarios de naciones unidas advirtió que si no se levanta el bloqueo a yemen sufrirán la hambruna más grande que el mundo ha visto durante muchas décadas con millónes de víctimas y por su parte unicef

por desnutrición aguda grave su director dice que añadir a ese número decenas de miles de víctimas es simplemente inhumano la semana pasada firmaron un comunicado unicef el programa mundial de alimentos y la organización mundial de la salud y decían que uno millón de niños podrían contagiarse de difteria no hay ni una sola vacuna en todo el yemen unos ciento cincuenta mil menores desnutridos podrían morir juntos dicen lanzamos

en la que ya es la peor crisis humanitaria del planeta y la onu vaticina una catástrofe dice que quince millónes de personas no cuentan con asistencia médica básica save the children tiene ahora mismo abierta una petición y dice

españa se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas del mundo en concreto el séptimo y es el tercer mayor proveedor de armas de arabia saudí

que el gobierno español sabe que arabia saudí uno de sus socios internacionales tiene las manos manchadas de sangre aun así

armas a la coalición españa tendría que incrementar dicen la ayuda y asistencia a los niños atrapados en conflictos armados en vez de vender armas y qué ha hecho españa en los últimos tres años españa ha destinado a yemen en ayuda humanitaria

y en el mismo periodo ha vendido a arabia saudí armas por un valor de mil millónes de euros o sea

más dinero en armas que en ayuda humanitaria hay que explicar algo más amnistía internacional

la autorización de la transferencia de armas incumpliendo las obligaciones como la regla de oro de no autorizar armas para cometer atrocidades no solo viola el tratado de comercio de armas

o asistir en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito

como cómplices podrían ser procesadas con arreglo al derecho penal internacional españa con el envió de armas a la coalición liderada por arabia saudí está vulnerando la carta de la onu la convención de ginebra y la declaración universal de los derechos humanos pero esto parece no importar a nadie

el tratado de comercio de armas la posición común del consejo y la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso que dice que las autorizaciones de exportaciones de armas serán denegadas cuando existan indicios racionales

que puedan exacerbar tensiones o conflictos que puedan ser utilizados con fines de represión internas o en situación de violación de derechos humanos creo que lo que les acabo de relatar en este supuesto de la ley sin ninguna duda el gobierno vasco por su parte está vulnerando la ley carta de justicia y solidaridad con los países empobrecidos

a las empresas el gobierno no colaborara de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción comercialización y financiación de armas tenemos varias órdenes de la consejera en los que cientos de miles de euros son destinados a través de programas como gaitek o hezitek a empresas dedicadas a la producción de material

puede parar el envío de armas hoy es lo que exigimos

no exigen esto en sus enmiendas hablan de todo un poco pero no quieren exigir al gobierno de españa que deniegue los permisos de exportación de armas de eso no dicen nada nosotros pedimos el mínimo de decencia que han tenido suecia holanda o valonia que han detenido las exportaciones también alemania en algunos casos

no éramos la autonomía con mayor capacidad de decisión de europa queremos saber qué empresas están en el ajo y hasta dónde están metidas y queremos decidir

y queremos que se deje de incentivar la industria armamentística

están dispuestos a hacer declaraciones sin efectos prácticos porque saben que desde aquí en todo caso podremos exigir al gobierno de españa que detenga esos permisos

un observatorio algo mínimo por qué no bajan aquí y nos dicen la verdad

nos dicen oiga que aquí lo que importa es que el negocio de las armas

muy lucrativo y que a ustedes lo único que les importa

es que esto está dentro de la legalidad aunque yo lo cuestione

si piensan eso por favor digan eso y no nos mareen

vamos a ver lecciones de eh bildu en relación con las armas y con el tráfico de armas con la utilización de las armas y con la letalidad de las armas ni una señor otero pero es que ya está bien qué hipocresía más grande mire si españa estaría vulnerando

todos esos tratados internacionales todas esas convenciones internacionales pues estarían

y no hay ningún procedimiento judicial internacional abierto de estas características

nosotros como grupo parlamentario nos fiamos del gobierno vasco

y desde luego quien tenga motivos para ir a los tribunales denunciar querellarse sobre el comercio internacional pues que lo haga y

en este debate independientemente de la gravedad de la situación sí que es cierto que la situación es muy complicada y muy compleja la situación en arabia saudí es muy compleja

martínez ya ha hablado también de la situación de de guerra de conflicto la situación geopolíticamente geoestratégicamente geoeconómicamente se hace

a eso se une una situación gravísima interna del propio

leía algunos artículos en los medios de comunicación han venido muchos estos días hablando de la situación interna de arabia saudí y

latente confrontación de dirigentes políticos incluso el propio heredero de la corona saudí con los clérigos la verdad es que

también en algunos medios de comunicación se hablaba de determinadas

algunas son actuaciones irrisorias dentro de lo qué es un gobierno o un estado en relación con políticas de juventud

cuestiones que tienen que ver con los contactos religiosos era como un acontecimiento increíble lo que sucedió el otro día cuando el príncipe heredero

mohamed salmán recibía a un cardenal cristiano maronita como

decenas de años que no recibía a un cristiano que un crucifijo no entraba por la puerta del palacio

de pequeños destellos de que algo puede estar cambiando se une la oposición de los clérigos la oposición de los religiosos y la represión interna que también existe o sea que en ese sentido

a la situación y a los contactos con arabia saudí

en definitiva en todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas ya sabemos por dónde pasan

estos días han sido abundantes las noticias y los artículos en diferentes medios y por diferentes expertos sobre la situación interna

guerra del yemen lógicamente mi grupo ya lo decía antes respalda y apoya las actuaciones legales

el gobierno de españa el gobierno vasco en relación con el comercio internacional

nosotros no vamos a ser contradictorios con las posiciones alcanzadas en la comisión de defensa

allá y nosotros también entendemos como decía antes que las empresas de tecnología militar y de defensa

cuestión que alguno puede criticar pero que hoy por hoy es así en relación con la venta de armas efectivamente nosotros

en nuestra enmienda de totalidad lo que valoramos y dónde tenemos la referencia en la posición común de la unión europea de ocho de diciembre de dos mil ocho por la que se definen las normas comunes que rigen el control

eso es algo de referencia además

ha manifestado que no tiene conocimiento de que material de defensa exportado por españa haya sido utilizado en la guerra del yemen

que gobierno de españa en relación con estas cuestiones si lo dice el gobierno de españa yo me lo creo y lógicamente

que denuncie al gobierno de españa o a las empresas esas que están operando pero en este caso yo lo que me fio

el informe presentado en el congreso sobre la venta de armas de la secretaría de estado de comercio relativo a dos mil dieciséis insiste en que todas las licencias relativas a munición

fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país pues eso lo dice el gobierno de españa y eso

criticarle por lo que el gobierno de españa valora en sus informes de comercio exterior y además y eso es objetivo la legislación

que se exporta eso también se ha puesto de manifiesto y las personas que están en las comisiones del congreso de los diputados han tenido oportunidad de debatirlo y de conocerlo

a otros países y al margen de algunas iniciativas la comisión de defensa sí que

facilitar la labor parlamentaria de control y seguimiento de esas ventas los grupos parlamentarios han pedido además al gobierno que detalle con mayor precisión el tipo de material exportado y que ofrezca información detallada sobre las ventas a los países en situación de estabilidad conflicto armado

violación de derechos humanos se va avanzando también en la información han solicitado y eso fue una propuesta del partido socialista un informe sobre el historial del receptor que analice un análisis exhaustivo del riesgo de desvío y de negar todas aquellas exportaciones a estados que haya una situación de represión de violencia política existan indicios de violaciones de derecho internacional hay que valorar que no se está quieto que pasos se están dando

los grupos parlamentarios en esa comisión de defensa coincidieron y aprobaron por mayoría la necesidad de mejorar el seguimiento las armas exportadas en el país de destino y potenciar el papel del ministerio de asuntos exteriores ahí está hay un trabajo

además uno de los elementos fundamentales es que la referencia de todas estas cuestiones ya no está

a favor de consensuar en la unión europea ese es el elemento un criterio común de los

y por eso nosotros nos hemos referido en nuestra enmienda al papel clave y el papel clave es la unión europea es la unión europea a través de sus diferentes

las posiciones comunes en el consejo europeo las actuaciones de la comisión europea

importantes como son las de la alta representante en relación con

esa es nuestra referencia nosotros nos hemos centrado en los trabajos de la unión europea en su resolución de exposición común y trabajo en esas claves y lo que se decida en la unión europea en relación

exigentes de embargos de posiciones duras es lo que nosotros respaldaremos y defenderemos y respetaremos lógicamente independientemente de que pueda

de la unión europea por eso nuestra enmienda a la totalidad iba dirigida a que el parlamento vasco asume como referencia en relación con la situación de yemen y la responsabilidad de arabia saudí lo ponemos de manifiesto en la grave situación humanitaria la resolución del parlamento europeo de trece de septiembre de dos mil diecisiete sobre las exportaciones de armas en relación con la aplicación

ahora se está preparando otra resolución del parlamento europeo sobre la situación humanitaria en el yemen que esperemos que

a la unión europea para que promueva eficazmente el cumplimiento del derecho internacional humanitario según lo previsto en las directrices pertinentes de la unión europea y destaca en particular la necesidad de la unión europea en su diálogo político

y en el caso de que tal diálogo no obtenga resultados valore otras medidas conforme a las directrices de la unión europea para fomentar la observancia del derecho internacional humanitario bueno
son pronunciamientos de la unión europea que nosotros traemos a la aprobación a esta cámara muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

invitados que hoy nos acompañan quiero expresarles mi comprensión y mi solidaridad con lo que están sufriendo les entiendo bien soy víctima directa del terrorismo yo he tenido que asistir a entierros

y de ciudadanos vascos reventados por bombas y asesinados con pistolas las mismas que usa arabia saudí

empatizar solidarizarme y además dedicarles una reflexión si me lo permiten y es que diferencien

la solidaridad y la defensa de los derechos humanos cuando van cargadas de valores y aquellos que todavía

no reconocen el daño causado y se siguen moviendo en un segmento de intolerancia en relación a lo que ha pasado muy recientemente y estamos tratando de superar

este país el país vasco no tenía ninguna guerra vivía en democracia y sin embargo compartía ubicación con muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen las manos manchadas de sangre de una sangre que todavía

el comercio de las armas su uso contra las poblaciones civiles

de los derechos humanos ha provocado en el pasado y lo sigue haciendo en el presente el posicionamiento de este parlamento ahora más focalizado en la situación de yemen permanentemente atacada por arabia saudí y su coalición la iniciativa amplia de podemos a la que se suma en el debate la parcial de bildu

y lo hacemos saludando la iniciativa y atendiendo a la dimensión de la misma

su utilización para vulnerar derechos humanos para empobrecer a millónes de personas para hacerlas huir de sus países o para dirimir intereses económicos y militares

y utilizar nuestra capacidad de influir para dificultar y evitar siga ocurriendo en lo que va de siglo treinta nuevas guerras se acumulan a las que vienen del siglo pasado rusia china y estados unidos aparecen en ellas asia áfrica américa y europa son sus escenarios el terrorismo se mueve en ellos como pez en el agua decenas

centenares de miles de personas combatiendo millónes de personas huyendo estamos quizás ante una

estamos quizás ante otra formulación de una tercera guerra mundial

y afecta al mundo entero y hay que tomar compromiso efectivamente la situación afecta al mundo entero en su economía en sus oportunidades en su progreso

en la convivencia entre diferentes en la tolerancia y en la solidaridad

está plagado de organismos de tratados de posiciones comunes de resoluciones y de buenas intenciones pero que también está muy escaso de resultados

las guerras sirven para hacer crecer el odio y hacer fracasar la integración para facilitar la recuperación de la extrema derecha

para que un americano un ruso y un coreano jueguen con el mundo

lo hagan sobresaltarse y a veces temblar hay más de seiscientos millónes de armas en circulación en el mundo hay más de ciento veinte lugares donde se mata a diario hoy en el mundo hay más oportunidades para disparar que para comer y todo lo que se puede hacer para frenarlo y cambiarlo hay que hacerlo europa

los países más pobres son los más castigados los más necesitados son los más machacados

es dar oportunidades para su utilización las iniciativas y las enmiendas presentadas todas tienen posiciones en común se habla de la solidaridad con yemen de la condena a arabia saudí del control de armas de la limitación de venta de armas de ayuda humanitaria de más intervención de europa y de sus países la enmienda conjunta que presentamos el partido nacionalista vasco y el partido socialista tiene dos virtudes con compromiso en esos aspectos el primero incluye

la segunda virtud es que se mueven en un escenario acorde con nuestras competencias que obviamente son limitadas y además relacionadas con la iniciativa europea

stop a las armas y la defensa de los derechos humanos

una dificultad que son las referencias a las actividades comerciales ajenas a las armas las nuevas competencias que exigen también una reforma constitucional y que se plantean por parte

respecto a las referencias a las actividades comerciales ajenas a las armas yo creo que había que hacer una observación importante distingamos los gobiernos en guerra los gobiernos en conflicto con las poblaciones de esos países las relaciones comerciales están relacionadas con los ciudadanos de esos países no exactamente con los gobiernos no principal ni prioritariamente con los gobiernos sino con las poblaciones de esos países en relación

y lo que son competencias del estado y hoy por hoy el puerto de bilbao es un puerto de interés general competencia exclusiva del estado reflejado en la constitución española y que puede ser modificado porque para eso está una comisión de reforma constitucional propuesta por nosotros y acordada en el congreso de los diputados en yemen hay treinta y uno millónes de habitantes esos treinta y uno millónes de habitantes tienen derecho a la automoción al ferrocarril a la petroquímica

a la ingeniería al transporte y a la logística internacional a la moda

al agua a las energías renovables es decir a los sectores con los que hoy comercializa euskadi en una parte y también españa

en españa hay diecisiete comunidades autónomas de las diecisiete catorce tienen relación directa en armas con el mundo catorce solamente extremadura la rioja y no tienen ningún comercio de armas el resto las tienen todas

y en los ayuntamientos de esas comunidades autónomas gobiernos diversos gobiernos plurales gobiernos conservadores y gobiernos progresistas de la derecha y de la izquierda y todos ellos tienen relaciones comerciales

serio en el que no cabe hacer una cosa en un sitio y recomendar otra en el otro

ver los márgenes de la política y tratar de actuar en esos márgenes de la política por eso nosotros lo que hemos hecho en esta iniciativa ha sido poner de atención la defensa de los derechos humanos la solidaridad con quienes están sufriendo el terror lo macabro de

estamos totalmente de acuerdo con que hay que intervenir el comercio de armas con que hay que hacer embargo efectivo con que hay que

las armas que pueden tener en algún caso una connotación de defensa pero que en otros casos vulneran los derechos humanos estamos totalmente de acuerdo con todo ello

una enmienda de sustitución que contiene el setenta y cinco por ciento de lo que se ha propuesto por parte de podemos fundamentalmente

de lo que estamos tratando aquí hoy estamos de acuerdo ahora es decisión de esta cámara elegir entre una gran declaración de máximos que quede en la papelera o entre una declaración

política suficiente que produzca fuerza que produzca unidad

influencia en este aspecto que estamos tratando no solamente en euskadi y en españa sino también en el marco de la unión europea muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

ni la situación de catástrofe humanitaria que sufre yemen

en el discurso de hoy sí habiendo copiado nuestra enmienda a la totalidad berbotsa hori esanda

zer gertatzen den a mi entender lo que estamos viviendo o lo que están viviendo y sufriendo sobre todo la población de yemen es una guerra fría entre dos bloques

apoyando los insurgentes chiís en el norte de yemen en aquella época su jefe juti es el que dio su nombre después a la guerrilla

y político chií líder de la insurgencia en junio de dos mil siete después del alto el fuego aceptado por las dos partes

en aquel momento y la insurgencia creo recordar que uno de los comandos suicidas

dos guipuzcoanas que estaban en ese convoy turístico bueno todos sabemos que el año dos mil once empieza la primavera árabe que empieza en túnez pero se expande a otros países de áfrica del norte

está forzado a entregar el poder a su vicepresidente este organiza un gobierno de unión nacional

convoca todos los partidos para redactar una nueva constitución que es aprobada a mediados del año dos mil catorce la guerrilla vuelve a atacar y esta vez con su antiguo enemigo con el presidente

aprobó seis resoluciones y dos declaraciones pidiendo el fin de la violencia de la guerrilla la puesta en libertad del ministro de defensa que habían secuestrado la liberación de todos los presos políticos

y la devolución de todas las armas que habían robado al ejército y que eran muchas esto es someramente lo que pasó en aquella época y nosotros ya a inicios del año dos mil dieciséis no esperamos esta iniciativa de hoy en día

ya denunciamos los bombardeos de la coalición árabe liderada por arabia saudí y pedimos que de inmediato cesaran las violaciones de los derechos humanos

y si en febrero del año dos mil dieciséis no teníamos ningún problema para criticar y condenar dichos bombardeos tampoco los tenemos hoy en día lógicamente arabia saudí o cualquier otro país que venga a atropellar

en cualquier parte del mundo ahora bien si como ustedes exigen hay que romper con arabia saudí yo pregunto por qué no romper con venezuela por qué no romper con china que también son clientes
de las armas producidas en el estado español isiltasuna mesedez y que tampoco son especialmente modelos

de los derechos humanos por qué no romper con otros clientes como irán que es parte involucrada en este conflicto

todos los días en siria y que también es cliente de las armas producidas aquí y lógicamente

y además fabrica y vende a arabia saudí las armas que están utilizando en los bombardeos de yemen

que nos parece mucho más completa y acorde a la realidad pedimos el fin inmediato del bloqueo que no habéis ni mencionado en vuestro texto ni en la enmienda transaccional

humanitaria la que está ocurriendo allí le estamos pidiendo tanto al gobierno vasco

que de inmediato entregue una ayuda humanitaria de urgencia

a aquellos estados en los que haya una situación de represión interna y existan indicios racionales de su uso

acometer graves violaciones de derecho humano internacional

es más bien del gobierno español y la unión europea y el grupo de eaj pnv

presentó el pasado cuatro de septiembre una batería de veinte propuestas de resolución

de controlar mucho más la venta y el comercio de las armas y se pedía entre otras cosas

se proporcione información detallada en las operaciones autorizadas en relación con países

conflicto armado o en los que se cometen violaciones del derecho internacional

hacia países con historiales de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario se incluyan los informes de evaluación de riesgo las medidas adoptadas conforme a lo previsto en el artículo siete punto dos del tratado sobre el comercio de armas de naciones unidas y toda la batería

no tengo tiempo de resumir aquí qué hizo eh bildu

una vez más no habéis trabajado en absoluto donde tenías posibilidad de trabajar y donde están las competencias en este caso nada podemos sí podemos sí trabajó un poco la materia e hizo propuestas que se aprobaron en parte como las nuestras

si ustedes pretenden sistemáticamente traer aquí los debates a la cámara que poco

como euskadi pero dónde hay que trabajar realmente

eskerrik asko sabía que iba a salir rusia venezuela me ha faltado irán

ni la posición común de la unión europea que si la cogemos en su integridad incluso hasta nos vale

a la unión europea porque no se implementa y españa tampoco está implementando esa posición común ese es el problema por tanto no nos hable de legalidad cuando estamos hablando de que no se cumple esa legalidad

humano en cuanto a la presencia de armas

en yemen por tanto tampoco vamos a entrar ahí como decía el parlamentario otero tenemos el ejemplo de balónia podríamos estudiar si nos sirve algunas de las cosas que hacen allí

simpaticen tanto le ofrezco que vote a favor o que votemos por puntos lo que esté de acuerdo de nuestra propuesta

lo que ha relatado aquí es cierto lo que ustedes han sufrido y lo que ha sufrido el conjunto del pueblo vasco pero eso no es óbice para que ahora permitamos que

en el extranjero no mezclemos temas que no hay que mezclar no hagamos juego

de temas porque el problema yo creo que tanto partido socialista como el pnv han mencionado ese tema con arabia saudí no es que el bloqueo que estamos pidiendo afecte al problema del al pueblo de arabia saudí

de comercio con ellos con ese gobierno lo que va a hacer es ahogar a ese pueblo ahogar a las mujeres y ahogar

populares de arabia saudí por tanto si están de acuerdo rompemos esas relaciones comerciales evidentemente arabia saudí no se va a sentir resentida en su economía porque euskadi rompa con arabia saudí pero nosotros sí que debemos un avance ético y humano

nos honrará como pueblo como parlamento como gobierno que hagamos ese tipo de cosas porque lo queda en la papelera desgraciadamente son las típicas declaraciones de que condenamos que apoyamos que solicitamos

pero sí que vamos a ayudar hacía ese tema señor aguirre yo

digo exactamente las mismas cosas queremos que como autonomía como euskadi tengamos otro tipo de relaciones comerciales otro tipo de relaciones

de esto pero podemos cambiarlo y podemos mejorar y queremos que euskadi sea punta de lanza pensaba que además que iba a ser otro

que se iba a utilizar sinceramente por parte de algunos de los grupos pero es que

en este punto es el vocero del partido de uno de los partidos que apoya al gobierno un gobierno que demostrado en papeles subvenciona

incumpliendo una ley de este parlamento eso es lo que estamos denunciando en este momento eso es lo que queremos y lo que ustedes no se atreven a firmar ni siquiera a votar en este parlamento los que estáis poniendo los que están alfombras rojas a la industria militar también en euskadi industria militar que acaba bombardeando al pueblo iraní

es igual de sincero que yo en esa solidaridad y en ese condena

eso no es compatible con criticar la posición que tiene mi grupo

sino a ese punto último de vuestra resolución de su resolución perdón que apela a reconocer el papel de las ong y de la sociedad civil que están reclamando precisamente cosas muy similares reclamando nosotros y creo que no es el día para hablar de venezuela el lunes hablaremos de venezuela si quieren denúncienlo presenten una resolución impidiendo que armas vasca vayan a venezuela hablaremos sobre la posible vulneración de derechos humanos o no que se producen en venezuela venezuela es una democracia perfectamente homologable y no lo digo yo

unidas y no vamos a mezclar el debate aquí ahora de venezuela con arabia saudí porque venezuela no es un país en guerra no mezclemos no situemos rusia no es un país en guerra

estamos hablando de lo que nosotros y nosotras podemos hacer aquí en euskadi sobre este tema

decía un gigante general tu tanque es más fuerte que un coche arrasa un bosque y aplasta

un defecto necesita un conductor general tu bombardero es poderoso

que un elefante pero tiene un defecto necesita un piloto general el hombre es muy útil puede volar

pero tiene un defecto puede pensar y se debe pensar pensemos pues si queremos un país

munduan yo lo tengo claro nosotras en nuestro grupo lo tenemos claro la euskadi de ese desarrollo humano

ejemplo tenga competencias para hacer algo o no las tenga seamos valientes pensemos actuemos eskerrik asko

es un pequeño altar aguirre jauna el veintiocho de diciembre veintiocho de diciembre

y el diez de enero se aprobó una subvención de tres millónes de euros

desde que se aprobó la ley se está incumpliendo que no sabe cuáles son las prioridades muy fácil una exigencia clara de este parlamento al gobierno de españa para que deniegue las solicitudes de exportación de armas a arabia saudí y que empecemos

que hay mucha y está lucrándose mucho con la guerra de arabia saudí la coalición contra yemen es muy sencillo

señor prieto por favor o sea directamente usted miente usted habla del setenta y cinco por ciento de acuerdo

y les dije que después de llegar a una enmienda de transacción nos parecía importante que mañana mandemos un mensaje de unidad

así que dejamos la puerta abierta tanto a aportaciones o a que mañana votemos por puntos si ven que no les convencen algunas de nuestras peticiones todavía nadie me ha respondido a este correo electrónico el señor barrio señor prieto y el señor aguirre los tres destinatarios así que ahora no venga con que hay un porcentaje de acuerdo

y otra cosa le voy a decir no es culpa de este parlamentario ni de este grupo parlamentario que está hasta aquí comprometido con la construcción de la paz en este país y en todo el mundo

si ustedes tienen partido popular partido socialista y partido nacionalista vasco problemas para explicar su postura en la guerra de yemen y en la venta de armas de la coalición arabia saudí no es nuestra culpa

y de hecho mis últimas palabras no las utilizaré para alimentar discusiones estériles yo prefiero dirigirme

se le hace insoportable lo que está pasando en realidad a quien voy a dirigirme es quien quiera escuchar y tengo que confesar que estoy reventado

y alguien pensará que pues bienvenido a la real politic y me cuesta

que no sabe hacer esta política cinismo y que sigue pensando que si tiene algún sentido estar aquí es precisamente para sacar iniciativas como las de hoy

que intentar hacer ese poquito que se puede hacer desde aquí contra la guerra aunque sepamos que el problema de la guerra es infinitamente mayor

y hoy me gustaría poder decir que desde este parlamento lanzamos un mensaje firme

y al abuso pero no puedo decirlo y me parece que este parlamento en su cobardía se vuelve pequeño

seguir la pista a la industria militar no solo es difícil es duro es muy duro

y durante el tiempo que llevo detrás del tema pues siempre hay algo que te anima y en este caso ha sido una canción de una cantautora colombiana

pues lo único que me queda para ofrecer es una canción y el compromiso de perseverar

se llama la autora al poco de escribir la canción explicaba que la escribió pensando en tantos inventos maravillosos que ha inventado la gente a través de la historia con el único objetivo de hacer la vida más feliz

soñando con que fuera posible que dedicáramos nuestro talento solamente para esto y a la guerra no le dedicáramos ni un minuto de nuestro tiempo y la canción dice así para el viento una cometa para el lienzo un pincel para la siesta una hamaca para el alma

una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y al oído

para la guerra nada para el cielo un telescopio una escafandra para el mar un buen libro para el alma

para el verano una pelota y barquitos de papel un buen mate para el invierno para el barco un timonel para la guerra nada

un poema para el mar para el fuego una guitarra y tu voz para cantar para el verano bicicletas y burbujas de jabón un abrazo par la risa

una canción para la guerra nada para el cielo un arcoíris para el bosque un ruiseñor para la guerra nada para el campo una amapola para el mar

para la guerra nada para la brisa una pluma para el llanto una canción para la guerra nada

la luna para calentarse el sol y para la guerra nada

yo me reitero en la primera parte de lo que yo he hablado en mi intervención inicial es decir del grupo eh bildu no podemos recibir ninguna lección de nada este canto a la no guerra que podemos suscribir todos desde luego

para cantarlo es un portavoz como el que acaba de intervenir entendemos que en esta cámara hay personas ha habido personas asesinadas por la violencia de unos fanáticos que pensaban en una guerra que su grupo todavía no condena recordarnos a fernando buesa recordamos a gregorio ordoñez a enrique casas en ese sentido hay derecho a escuchar con ese cinismo y con esa ironía

tenemos que decir que cuando eh bildu gobernó la diputación foral de gipuzkoa ayudas y subvenciones se daban a empresas armamentísticas y de tecnología militar y eso lo tiene que reconocer y en ese momento no dijeron nada muchas gracias

un fin noble un fin importante un fin de la dimensión como el que hoy se aborda aquí es bueno morderse la lengua yo me la he mordido en mi primera intervención

me interesa bastante más que haya un acuerdo en este parlamento para que se pueda producir

y rotundo contra las guerras contra las armas en favor de los derechos humanos pero claro lo que no puedo admitir es que

siempre pretendiendo dar lecciones en esa especie de conciencia vanguardista del mundo entero y usted se trague se coma

somos pacifistas y estamos contra la guerra pero no definimos para qué se utilizan los barcos

pero el equilibrio de la geopolítica y la paz mundial no puede caer sobre las espaldas de los trabajadores nosotros tenemos contradicciones porque tenemos conciencia

alcalde de cádiz apoyado por el secretario general de podemos el señor iglesias turión es decir el malo de los iglesias no el bueno que es pose y

por nadie en su formación política esto es su doble moral su doble lenguaje su doble ética esto es pero en fin usted

debates de este tipo insista en hacer cuerpo a cuerpo que lo tendrá y que sus contradicciones

aquí para que sean un poquito más humildes y quieran dar menos lecciones al mundo

cuando uno tiene mochila cuando uno tiene bagaje ahora cuando está empezando sobre todo se aprende algarak isiltsuna mesedez porque algunos de ustedes que ya

dónde han estado como conciencia hasta ahora y cuándo han tomado compromiso de verdad y se han destacado cuando aquí se han vulnerado derechos humanos permanentemente

lehen abisua no entiendo su concepto de democracia que quieren que les escuchen

tratan de boicotearla y tratan de montarse sobre encima de la palabra

tengan un poco de compostura compórtense que yo les he escuchado y anda que no escucho cosas que no tienen ningún fundamento político

ustedes que siempre hacen alarde de la defensa de la palabra cuando se les contradice cuando se les pone ante su espejo cuando se les dice cosas que no les gustan procuran hacer pateos que en fin no son propios del comportamiento democrático y ético en una cámara

espero que me descuente el tiempo este de la interrupción de claqué que ha habido durante

usted tiene oído duro y vista corta porque yo le he respondido a su planteamiento político de su enmienda transaccional

que hay una parte de podemos y de bildu con la que estamos de acuerdo y en mi opinión

decir que por eso miento le he dicho en qué no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en limitar

porque recae y repercute negativamente no digo de las armas sino de todo lo demás porque recae y repercute negativamente sobre treinta y uno millónes de ciudadanos que se verían afectados por ello he dicho que no estoy de acuerdo

que es competencia del país vasco un puerto de interés general porque no es competencia del país vasco ahí está fundamentalmente la diferencia en el punto uno

se habla de un mayor control se habla de revocar las transferencias de armas y se hace a quien tiene facultad para hacerlo que es el gobierno de españa y la unión europea porque en el mercado de quien autoriza quien tiene capacidad para la autorización es el gobierno de españa bajo el control del congreso de los diputados y es también la unión europea bajo sus directivas por tanto nosotros nos hemos

hemos dicho todo lo que es sustancial en este debate

y usted tiene dificultades para aceptar posiciones diferentes a la suya también trata de investirse permanentemente en la verdad de las verdades y también se trata a veces de ocultar un pasado que realmente es oscuro oiga los derechos humanos

no se han inventado cuando usted es parlamentario en este parlamento ya existían y estaban vigentes en décadas anteriores y qué pasaba en décadas anteriores en este país que se vulneraban permanentemente esos derechos humanos

en toda circunstancia y en toda situación otros solo por conveniencia ustedes hoy no quieren tráfico de armas pero ustedes

para anular al que pensaba de forma diferente y quería vivir en libertad y en democracia

para ser creíbles tendrán que hacer un acto firme claro y responsable de rechazo de la violencia

en todo tipo y condición y por todos los ciudadanos hoy

hay todavía trescientos asesinatos que no están esclarecidos venga usted aquí a defender en defensa de los derechos humanos

en cualquier parte del mundo tampoco los bombardeos de la coalición árabe liderada por arabia saudí y

una breve nota de prensa del veintiséis de abril de este año por cierto ochenta aniversario

rusia ha llevado a cabo más de veintitrés mil misiones y alrededor

bombardeos en siria desde el comienzo de la intervención que fue en octubre de dos mil quince en dieciséis meses setenta y siete mil bombardeos

y si condenamos los bombardeos de yemen que no tengo ningún problema critiquemos también

y bombardea todos los días y me es igual que sea rusia estados unidos o cualquiera vamos a denunciar todos por igual la violación de los derechos humanos

hori berdin zaizue bost axola les da lo mismo porque yo también voy a mencionar aquí ahora al alcalde de cádiz

decía por si alguien tenía alguna duda este equipo de gobierno da su apoyo a cualquier iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la bahía de cádiz que no quepa la menor duda sobre nuestro apoyo a los astilleros de la bahía de cádiz respaldo y apoyo

están desarrollando para que el contrato de las corbetas se firme de la manera más

pero es que jorge suárez alcalde del ferrol ex militante de izquierda unida y dice exactamente lo mismo porque claro es en cádiz en puerto real y en el ferrol donde se van a hacer las corbetas

dará empleo a unas diez mil familias entre directo e indirecto eta otero jauna

y los no aludidos se sienten no aludidos evidentemente el señor prieto

en el marco de nuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres debemos asumir el reto

en la respuesta ante la violación contra las mujeres para ello se hace necesario contar con los medios y recursos que permitan visibilizar todos los impactos de la violencia

es necesario dar voz y protagonismo tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como las asociaciones en las que se agrupan reconociendo su legitimidad

esta reparación debe tener como objetivo la completa recuperación de las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres debe incluir por lo tanto la mejora de todos los servicios y sistemas implicados a través de su evaluación sistemática por tanto en el este marco de día internacional contra la violencia hacia las mujeres el parlamento vasco manifiesta bat

a la reparación de las mujeres víctimas de violencia para su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho

y en particular de los niños y las niñas por lo que ha de recibir

sus responsabilidades dentro de la comunidad asimismo reconocemos que la familia tiene una labor

de los y las menores y en la transmisión de valores en euskadi tomamos conciencia de la necesidad de abordar el trabajo con familias

las medidas orientadas a la protección de las mismas así como de las niñas niños y adolescentes han de ser medidas que atiendan y se adecuen a esa diversidad el parlamento vasco reconoce a la infancia y adolescencia como sujeto

y se compromete a seguir trabajando de forma conjunta para asegurar un desarrollo humano justo y solidario basado en el interés superior de los y las menores